en este difícil contexto mi único objetivo es que se respeten los derechos de todos mi deseo es restaurar la legalidad y la libertad de todos los ciudadanos

y la arbitraria tiranía de sus cabecillas es la cantinela que venimos escuchando a diario en boca de felipe sexto de españa de su primer ministro mariano rajoy con el aplauso del partido socialista y de ciudadanos

tercero de inglaterra en su primera alocución en el parlamento

de independencia de los estados unidos un acto ilegal a los ojos de la corona británica siete años más tarde

por su propia voluntad españa nunca en la historia ez euskal herrian ez katalunian ez cuban

mehatxu hori egiten diete porque aunque hayan pasado varios siglos en holanda en flandes en buena parte de bélgica

y es la figura que sirve para asustar a los niños porque aún se tiene en la memoria a las tropas españolas que entraron a sangre y fuego para reprimir las ansias

por cierto hace muchos años que aquellas tierras se liberaron de la tiranía de la corona española no sin grandes dificultades bide bat ez esango dizuet

esaldi famatu hura gogoratzen duzue apoyaré la reforma del estatuto que apruebe el parlamento catalán errepikatuko dut apoyaré la reforma

allá estaba esperando alfonso guerra que se vanaglorió después

pero a pesar de todo fue sometido a referéndum en dos mil seis y a pesar de que no participó ni la mitad del censo en el referéndum el estatut fue aprobado por la ciudadanía de cataluña luego llegó el recurso del partido popular incluida la recogida de firmas azuzando en todo el estado

para luego hablar de fractura social y tal y cual y luego llegó la sentencia del tribunal constitucional en el dos mil diez cepillando todo lo que alfonso guerra

y el mensaje a los catalanes y por ende a todos lo demás desde luego sí

fue contundente y claro pueden ustedes votar lo que quieran y recuerden que lo habían hecho en un referéndum con todas las bendiciones pueden ustedes votar lo que quieran porque nosotros haremos lo que nos dé la gana pueden ustedes votar lo que quieran porque nosotros haremos lo que nos dé

han hecho aquello que prometieron cuando se presentaron a las elecciones proclamar la república catalana que la ciudadanía

defensa de la legalidad señores del pp y señores del partido socialista hasta dónde están ustedes dispuestos a llegar

importa mucho robar urnas tampoco saltarse su propia constitución poca cosa declarar operaciones policiales secreto de estado tampoco

hasta dónde están dispuestos a llegar espainia bere

que apenas cubren quinientos metros y miles de personas en manifestaciones ocupan kilómetros pero pecata minuta no le doy casi ninguna importancia porque las manifestaciones

se soluciona muy bien quién tenía más peso o quién no mucho más me preocupa que se atrevan a falsificar documentos para desacreditar por ejemplo

la confusión y lo hacen porque saben que es la única manera de salirse con la suya es que cunda el desánimo entre los demócratas que cunda el desánimo entre los independentistas que no vayan a votar

los más de dos millónes de ciudadanos y ciudadanas que optaron por la independencia el uno de octubre no hay ni diplomacia ni prensa

a la hora de conseguir que acabemos hablando cada semana de cataluña por unas razones

pero hoy venimos perdóneme que le diga al debate de la nada de las urgencias de bildu

eso sí le reconozco que con una propuesta muy clara y concreta reconocer la república catalana ahora bien no sabemos si fue la que duró ocho segundos el diez de octubre

a partir del veintisiete de octubre pero en cualquier caso ese reconocimiento sería un acto solemne que no se va a producir y a sabiendas de ese resultado

se empeñaron en que ocupemos nuestro tiempo en debatir algo que no existe y eso no lo décimos los socialistas es que nadie

tanto sui géneris que hace usted nadie digo en ningún lugar del mundo

cree que se haya proclamado la república catalana se ha quedado en un intento haciendo ingeniería legal fuera de la ley que ya es de doctorado de ingeniería y de leyes y para eso se ha desmontado toda la arquitectura del autogobierno catalán la social la económica la que con tanto esfuerzo

se empeñaron en construir durante muchos años por eso no se lo cree nadie empezando por los independentistas incapaces en saber siquiera cuál de las esteladas les representa si la de fondo azul o la amarilla si la estrella roja o la blanca

que se ha desvelado como gran mesías que se refugia por cierto en europa para despotricar contra europa pueda ser el líder que guie ese mundo tras las elecciones como gran botín del periplo internacional

el aplauso entusiasta de la ultraderecha europea y el voto en contra incluso de sus amigos del parlamento flamenco y transforman un llamamiento a una huelga general

con el fin último de dificultar aún más si cabía la vida de los catalanes aun así bildu se empeña en llevar la contraria a los propios abogados de aquellos encarcelados

dice el defensor de los antiguos consejeros de esquerra republicana resulta evidente que los investigados no ostentan actualmente cargo ejecutivo alguno

se ha procedido en cataluña a la disolución del parlamento con el objetivo

de participación en el proceso electoral fijado por el gobierno de españa y la realidad catalana ahora mismo no tiene mucho que ver con la independencia pero sí con las obsesiones independentistas que son cosas distintas pero la realidad catalana por culpa de esas obsesiones es que cerca de dos mil empresas han cambiado su sede social

también el domicilio fiscal y otras congelan inversiones previstas en industria que genera miles de empleo

y que las familias y las cuadrillas evitan conversaciones para no enfrentarse entre sí y la realidad legal de cataluña

habrá elecciones autonómicas que tendrán las garantías legales suficientes y a la que podrán presentarse la totalidad de los partidos que lo deseen y parece que todos lo van a hacer sin que la defensa de la independencia sea impedimento alguno para el derecho activo

un empeño electoral en el que por cierto nos empeñamos los socialistas desde que empezó el desescombro de la autonomía en aquellos días nefastos de seis y siete de septiembre un empeño en el que se volcaron nuestros compañeros catalanes en un esfuerzo en el que también se empeñó el lehendakari

que tiene un president en el ejercicio del autogobierno la disolución de la cámara

lo aborto faltando a su compromiso de cumplir y hacer cumplir la ley faltando a su compromiso de servir a los catalanes a todos no solo a los que le votaron faltando a su compromiso con la palabra dada a nuestro compañero miquel iceta

y tenemos dudas sobre porqué faltó a su palabra quizás pudo ser porque nunca tuvo tal palabra

sumando una más a la multitud de mentiras que han acompañado todo el proceso cuando ya en realidad tenía un plan de fuga diseñado pero también pudo ser que faltara a su palabra

traidor de sus propios socios de gobierno por cierto una palabra la de traidor que no ha asustado a los alcaldes y alcaldesas del partido socialista de cataluña que lo vienen soportando

en vez de arrastrar a sus vecinos y funcionarios al abismo sin recibir por cierto ni un atisbo de solidaridad

los socialistas nos empeñamos hasta el último segundo en que no se aplicara el artículo ciento cincuenta y cinco porque eso significa que representantes legítimos de una comunidad autónoma se han saltado la legalidad que los hizo ser eso representantes de la ciudadanía

estaban como tales representantes y por tanto han dinamitado la autonomía que tanto costó recuperar

pero hubo que convocar elecciones por la renuncia del entonces president hoy todos por cierto están dispuestos a participar

sea capaz de hacer lo que no se ha hecho intentar ponerse de acuerdo entre ellos para proponer un acuerdo al gobierno de españa esa es la realidad

y por tanto su iniciativa permítame que le diga se ha quedado ya vieja antes de discutirla

a la obcecación permanente a traer todas las semanas por unas u otras razones este asunto que parece ser por cierto la única forma que ha encontrado bildu de hacer oposición de sacar la cabeza mediáticamente y de paso intentar poner en un aprieto al pnv una obcecación que acompaña ahora de pura obscenidad decidir con su dedo acusador

o no para gobernar euskadi que esa es otra de sus campañas es pedir carnets de gobernantes

y de lo que quisiera no acordarme pero me tengo que acordar todavía por desgracia sepan una vez más por si aún les quedara alguna duda que nosotros no admitimos ni vetos ni exclusiones

se excluya de las decisiones políticas como hizo en su momento pero tampoco vamos a admitir que ustedes quieran excluir a nadie no lo admitimos en el pasado y no lo vamos a hacer ahora

nos ratificamos en lo que hemos dicho en otras ocasiones la defensa del dialogo del acuerdo de la pluralidad y de la ley

y hoy ponemos voz una vez más a lo que vienen clamando en cataluña nuestros compañeros catalanes porque pensamos que ha sido el discurso más nítido a favor de la solución nuestra enmienda lo que recoge son las propuestas que hicieron nuestros compañeros en la última sesión que vivió el parlament antes de que puigdemont forzará a que el gobierno de españa lo disolviera el último intento del grupo de miquel iceta que se tiró a la basura

por una mayoría de esta cámara lamentamos que el gobierno de cataluña y una mayoría del parlament hayan hecho dejación de sus responsabilidades en la gestión del autogobierno de aquella comunidad

que ha conducido a la anulación del modelo de autonomía pactada hace cuatro décadas sin sustituirlo por ningún otro acuerdo esperamos que las elecciones del veintiuno de diciembre

permitan a las instituciones gestionar el autogobierno para que la legítima representación de la ciudadanía catalana determine su futuro de forma pacífica democrática y legal reconociendo la vigencia del estatut y de la constitución

y de negociación entre todas las formaciones políticas catalanas sin vetos ni exclusiones

mediante los mecanismos bilaterales existentes en un proceso de distensión y desescalada del conflicto político existentes instamos al conjunto de las fuerzas políticas a participar en el imprescindible proceso de reforma federal de la constitución

y sus singularidades sin perjuicio de que mientras tanto se acuerden medidas concretas para cataluña creemos que nuestra propuesta de soluciones políticas es así porque entendemos que es verdad que existe un conflicto político en cataluña y lo que proponemos son puertas de salida para el corto plazo

y sí los socialistas estamos convencidos de que una reforma de la constitución que reconozca las diversas realidades que conviven en españa también tiene que servir para cataluña ayer es verdad que echó a andar con demasiadas ausencias pero echó a andar

implicar mal que no sé si con mucho gusto al partido popular que siempre se ha tapado los ojos ante una realidad que ampliamente demandaba la sociedad

se ausentan mientras esto ocurre pedimos a esta cámara que no deje de mirar

una ciudadanía que hoy está atendida y que tienen quienes nos sentamos en estos escaños a políticos que cada semana llegamos a acuerdos aquí sobre sanidad sobre educación

y protección para quien menos tienen ese es el desarrollo del autogobierno que queremos reforzar nuestra situación afortunadamente es muy distinta de la catalana y eso tiene que ser un caudal a preservar los socialistas asumimos con orgullo nuestra cuota de responsabilidad en que esto sea así no hay nada que envidiar a la situación catalana señora iriarte nada y voy a terminar

poner una fecha mucho más reciente una cita de un convencido nacionalista catalán

tan costosamente reconquistado en una amarga carta por la deriva que tomaban sus herederos en el gobierno en abril del ochenta y uno josep tarradellas como ve bastante más reciente que jorge tercero se despedía con una reflexión

es demasiado pequeño para que desprecie a ninguno de sus hijos y lo bastante grande para que quepamos todos ese es el mensaje que nosotros queremos mandar a euskadi y a cataluña

egun on legebiltzarkideok hoy estamos asistiendo a un debate que como decía

vemos cosas que nadie creería pero que van a suceder realmente

hoy vemos a partidos que han visto una declaración unilateral de independencia y vemos a partidos que niegan

y para una cosa y la otra no han tenido que irse más allá de orión hoy vemos que da igual si han visto o no esa declaración unilateral algunos partidos de esta cámara discutirán entre ellos como si no hubiera un mañana

confiando y deseando con todo su corazón que todo esto se pierda en el tiempo como lágrimas en la lluvia

las barbaridades del gobierno del partido popular que han apoyado sin embargo

ninguna sorpresa tampoco más allá de que todos más o menos ya sabemos de antemano qué es lo que va a pasar en este debate más allá de que vayamos a volver a hablar de cataluña por tercera o cuarta vez en los últimos meses el tema en cuestión

creo que hoy en este parlamento vamos a ser el único partido

a utilizar lo que sea cualquier cosa para justificar su posición política y no lo vamos a hacer no porque no tengamos nuestra posición no lo vamos a hacer porque hoy aquí en este debate no resuelve

lo que no quita para que sí vayamos a hacer gala de nuestros principios nuestros principios democráticos y los principios de los derechos humanos

principios democráticos y derechos humanos para defender

otra forma de abordar la situación en cataluña sino para poder ofrecer hoy y mañana soluciones para intentar aportar con toda humildad un granito de arena a resolver los problemas y las tensiones

todavía y digo que con toda humildad porque creo que todas las fuerzas políticas hemos cometido errores en esto que ha sucedido la mía también

para nada y lo pueden comprobar a lo largo de esta intervención es simplemente ser honesto

hoy lo que toca es hablar a la ciudadanía a la ciudadanía vasca y a toda no solo a una parte y hablar como lo haría ella decir lo que una inmensa mayoría diría y hacerlo porque de verdad sentimos que lo que una mayoría de vascos y vascas sienten independientemente de lo que piense o no sobre la independencia del derecho a decidir

hoy vamos a volver a debatir sobre cataluña porque algunos quieren pescar en río revuelto y previsiblemente de este debate no va a salir un solo acuerdo y es triste porque

lo hemos intentado poner realmente fácil nosotros hemos hecho

pero eso hoy en este debate donde todos sabemos de antemano lo que se busca

parece que da igual y es que de nuestra enmienda se nos ha dicho por parte de alguno que es muy estatal

hablar de principios democráticos hablar de diálogo de soluciones pactadas de la opinión de amnistía internacional o del alto comisionado de naciones unidas para los derechos humanos es un concepto muy estatal pero saben qué les digo que lo que hemos hecho hoy en elkarrekin podemos estamos convencidos de que precisamente es lo que haría cualquier ciudadano o ciudadana vasca lo que ha sentido una mayoría plural de vascos y vascas

pena y rabia de ver que se han vulnerado derechos humanos y principios democráticos fundamentales y por eso nuestra enmienda

como un repaso cronológico bastante imparcial por cierto y los va valorando conforme lo han ido valorando instancias neutrales y objetivas valorándolas como las valora la mayoría de vascos y vascas y ahora voy a pasar a detallar

una actuación policial hiriente hiriente en todos los sentidos

el consejo de europa o el alto comisionado de las naciones unidas para los derechos humanos

en el uno de octubre de verdad el partido popular y el partido socialista visto lo que han dicho organizaciones y organismos de derechos humanos vais a negar esto lo pregunto de verdad o sea me gustaría que se me respondiera

por suerte han podido salir bajo fianza

al servicio de un partido político y no en favor de la ley y el derecho autos que dictan prisiones preventivas incondicionales saltándose toda jurisprudencia

imposibles de verdad que para el pnv es difícil

una actuación judicial sin garantías desproporcionada y excesiva no es relevante esto no es relevante que esto aparezca en lo que hoy salga de este parlamento

cuando la separación de poderes y los fundamentos de un estado de derecho han saltado por los aires la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco se han cargado el autogobierno en cataluña sí se han calzado

sí señores del pnv de verdad que el parlamento vasco no tiene interés en denunciar esta barbaridad y que esto salga reflejado en una enmienda de transacción de verdad que el parlamento vasco no tiene interés en sumar su voz

denunciando que esto vulnera el derecho fundamental de participación política de la ciudadanía catalana

la famosa declaración unilateral de independencia miren ya no voy a entrar a si la

ya tuvimos un debate prácticamente surrealista entre el señor erkoreka y la señora iriarte la semana pasada pero les proponemos algo tan sencillo como apoyar

observador internacional imparcial que dijo que el uno de octubre no hubo un referéndum con garantías de verdad que no vale

masiva sí muy masiva pero no un referéndum no se puede proclamar nada

a buscar soluciones políticas que permitan una consulta ciudadana pactada y legal invitar a que el veintiuno de diciembre haya unas elecciones sin amenazas y con todas las garantías de verdad que este parlamento no tiene interés en llamar al diálogo en llamar a la participación ciudadana en llamar a que la ciudadanía pueda expresarse sin amenazas y con garantías

tan de sentido común parece que hoy no tienen cabida porque todo va a girar y todo gira en torno a si hubo una declaración de independencia o si no la

sinceramente creo que lo importante es otra cosa lo importante hoy es señalar que hay cosas inadmisibles

deberían haber sucedido y que jamás deberían repetirse y hoy de esta cámara es probable que no salga nada más que discursos

no se pueden hacer de cualquier modo que si por un instante dejamos de mirar a cataluña para mirar a nuestro país a euskadi tenemos una serie de aprendizajes muy claros

que el derecho es un principio democrático insoslayable

y que cuando estas cosas se separan no funcionan que es posible decidir y hacerlo sin fracturas sociales pero que eso implica hacerlo de forma legal

y que para decidir sin fracturas social las claves son preguntas claras garantías democráticas para todas las partes y mayorías cualificadas o reforzadas para tomar cualquier decisión no vale la mitad más uno

que dijo yo tengo claro donde estar implicada en la construcción

que nos den más democracia y no menos

nos sirva como la mejor herramienta de construcción de consensos eskerrik asko

señor lehendakari señoras y señores consejeros señorías

hasta esta misma mañana que usted iba a retirar la proposición no de ley

han pasado muchas cosas desde que ustedes la presentaron y hemos conocido y hemos tenido también una información

desde que ustedes la presentaron que cambia el escenario político y que por lo tanto también altera los posicionamientos políticos o así debería de ser salvo que alguien se atenga a una posición política independientemente de lo que pase

pensaba que lo iba a retirar primero porque nadie en el ancho mundo es verdad que salvo

pero nadie en el ancho mundo y por lo tanto tampoco en europa ha reconocido

independiente de cataluña nadie nadie ha reconocido la república de cataluña y parece razonable también porque no cabe un pronunciamiento es exótico ese pronunciamiento sobre lo que no tiene existencia en el ordenamiento jurídico entre otras cosas

porque si al continuo incumplimiento al reiterado incumplimiento de

al incumplimiento a la inobservancia de los propios informes de los letrados del parlament de cataluña

independentistas allí no fuera suficiente los efectos sociales los efectos políticos

que toda esta aventura y todo este despropósito en el que han embarcado a los catalanes los independentistas en cataluña han sido efectos terribles terribles

políticos que qué quiere que le diga a mí me importa bastante poco sino para los ciudadanos son efectos terribles sociales económicos

por esta aventura y este dislate como por lo tanto también que se pretenda que este parlamento que esta cámara se pronuncie a favor de algo que está generando una polémica y un enfrentamiento social inédito en la historia reciente de cataluña un enfrentamiento y un distanciamiento político inédito también en la historia reciente de cataluña y un perjuicio económico y social

en las personas fundamentalmente en cataluña es un dislate pretender que este parlamento avale semejante aventura y semejante dislate

y hoy sabemos que los políticos separatistas en cataluña estaban preparados para hundir la economía estaban preparados para dividir a la sociedad pero no estaban preparados para la independencia esta es la realidad cruda

y la que desde nuestro punto de vista no podemos obviar en esta cámara

y vaya que lo han demostrado dos mil cuatrocientos empresas catalanas

y con lo que el riesgo y la amenaza para la economía catalana y por lo tanto para los ciudadanos eso representa cerca de mil empresas han cambiado ya el domicilio fiscal saliendo de cataluña a otras regiones y a otras comunidades autónomas de españa con lo que eso significa para la recaudación en impuestos para en cataluña con lo que eso significa para las políticas sociales

de los ciudadanos cerca de mil empresas han trasladado su sede fiscal fuera de cataluña la economía se resiente es verdad más del cuarenta por ciento de las reservas hoteleras esto probablemente alegre a la cup entre otros

y la economía de los barceloneses han renunciado ya a esas reservas se han ido de cataluña planeta gas natural caixabank sabadell abertis catalana occidente cellnex applus edreams odigeo bimbo codorniu

entre otras solo las primeras trece cotizadas que cambiaron de domicilio tienen una capitalización conjunta de ochenta y cuatro mil millónes de euros alguien es capaz de aventurar

no solo para la economía catalana insisto sino para las economías familiares de los catalanes esta aventura que ustedes hoy piden que respaldemos en este parlamento decía que también es verdad estaban preparados

el deterioro progresivo de la convivencia en cataluña se podrá maquillar se podrá justificar de la manera que sea y se podrá

el enfrentamiento entre los ciudadanos pero es dramático comprobar y padecer junto con los catalanes el deterioro de la convivencia social y política

y a lo que nos abocan estas aventuras separatistas y les decía también que no estaban preparados para la independencia

obviamente desde un punto de vista jurídico no admite ningún tipo de discusión que era un dislate de imposible materialización pero es que ya sabemos en el colmo del despropósito

de escuchar a lo largo de estas semanas a prebostes a dirigentes

recular dar marcha atrás y sin sonrojo reconocer cosas como la siguiente clara ponsatí la exconsejera de cultura

no estábamos suficientemente preparados para la independencia señor toni comín también exconsejero

porque así tenías a la gente más cohesionada la vanguardia hace dos días joan tardá en el periódico de cataluña hace también dos días

carles campuzano se necesita más tiempo las mayorías sociales también en el periódico de cataluña en estos días pero en manos de quién están los catalanes en manos de quién han estado los catalanes

a dónde han llevado la política la convivencia la economía estos irresponsables que son capaces

y defender una supuesta arcadia feliz y a los dos días decir que no que era mentira todo que marcha atrás que no estaban preparados

ni la estructura suficiente para hacerlo y que además judicial y legalmente es un imposible y que divide a la sociedad tal es así

llegan a sumar de electorado en cataluña es verdaderamente inquietante y es verdaderamente inquietante

es inquietante para el conjunto de los españoles que evidentemente no asistimos a este vodevil en cataluña

porque hay quienes quieren que en euskadi también nos embarquemos en un camino similar

mejor cuanta más tensión exista y cuanto más enfrentamiento exista mejor

lo que hoy no va apoyar me alegro que rectifique en el parlamento vasco resulta inquietante que hay quien quiera reírle las gracias a estos independentistas y a estos irresponsables por lo tanto

de la aplicación del artículo ciento cincuenta y cinco que ha recabado un amplio respaldo político lo que ha venido a suponer es un alivio absolutamente

de lo que ha supuesto la aplicación ha sido parar este despropósito y convocar elecciones autonómicas otros por cierto señor egibar lo intentaron de otra manera pregúnteselo al señor lehendakari

otros muchos intentaron que las elecciones en cataluña se celebraran a iniciativa

insisto pregúntelo usted al señor lehendakari y la responsabilidad de cualquier político que tenga talla de estado y que no quiera asistir impasible

y a este deterioro insoportable de las instituciones en cataluña por responsabilidad de los separatistas tiene que intervenir y nuestro estado de derecho tiene recursos cuando alguien

y lo ha hecho a través de la aplicación de un recurso constitucional como es el artículo ciento cincuenta y cinco insisto con un amplio respaldo político

socio de su gobierno en el gobierno vasco por la aportación también de ciudadanos por la aportación de foro asturias por la aportación de otras formaciones políticas también

ve el futuro el inmediato electoral y democrático con la convocatoria de unas elecciones autonómicas y a nosotros no nos cabe la menor duda pero si no todos tendremos que remar a favor de que el día después de las elecciones en cataluña los políticos en cataluña de una vez por todas empiecen a dedicarse a solucionar los problemas reales de los ciudadanos y no a generarles nuevos problemas

con todo este despropósito y termino señora presidenta

que creemos que existe en euskadi frente al contagio no sea superado

no podemos embarcar no tenemos derecho a embarcar a ninguna sociedad tampoco a la vasca desde luego a la catalana y a la española en semejantes derivas que lo único que provocan es empobrecimiento

son los más débiles cuando la economía se resiente cuando los políticos son tan irresponsables como lo están siendo los dirigentes en cataluña quienes más sufren son las familias y

lo peor lo peor de todo es que

son los ciudadanos los que recogen los vientos de estas tempestades tan irresponsables en euskadi

y si son capaces de seguir seduciendo a lo mejor por aquello de la foralidad en gipuzkoa lo consiguen

eskerrik asko lehendakari andrea zurekin hasita sémper jauna a lo que no estaban preparados

era a la aplicación injusta y antidemocrática del ciento cincuenta y cinco que lo han hecho saltándose su propia ley y si no fuera tan terrible lo que están haciendo me daría casi la risa oír a su partido hablar de defensa de la legalidad su partido el pp que ayer mismo se convirtió en el primero partido de todo el estado en estar formalmente procesado en una causa

el primero recordará usted que las ilegalizaciones de los partidos vascos nunca fueron por causas que no fueran especiales o causas políticas

el pp está procesado por encubrimiento entre otros graves delitos por no hablar de todos sus tesoreros de centenares de cargos

la risa si no fuera tan grave lo que me está diciendo señor pastor ustedes no aceptan vetos

es una vieja técnica la de culpar a la víctima como hacen ustedes señalando a las legítimas autoridades de cataluña como las responsables del ciento cincuenta y cinco pero no se equivoque el ciento cincuenta y cinco lo aplican ustedes ustedes votaron a favor de que se aplicara de que se aplicara de una manera

en el senado junto con ciudadanos y el partido popular y yo entiendo que tengan ustedes

y usted me habla de algunos alcaldes de cataluña pero yo le voy a hablar de otros alcaldes de cataluña por ejemplo de jordi ballart alcalde de terrassa tercera ciudad más grande de cataluña que como bien sabe ha roto su carnet del psc y ha dimitido

sus votantes semejante atropello señor pastor

lo preocupante es que le preocupa la legalidad pero le preocupa la legalidad española begira harrituta uzten nauzue

pues nos hablan de las garantías del uno de octubre del referéndum pactado pero me quiere decir usted pactado con quién

no le ha oído usted al señor sémper será pactado con el señor rajoy

con el señor rivera no le ha oído usted al señor pastor será con el señor sánchez

con quién quieren pactar con quién quieren pactar entonces no nos líen porque luego además ustedes han aplicado su particular ciento cincuenta y cinco

destituyendo de su cargo al secretario general de cataluña

en fin las cosas quedan un poco desdibujadas en su actuación

hurrengo egunean titular hauek cataluña declara la independencia dio lehenengoak bigarrenak era enrrebesatuagoan un parlament fracturado declara de la independencia y rajoy responde con elecciones

desde el respeto personal que sabe que le tengo señora iriarte

es verdad pero falseado que no resiste ni un mínimo rigor

como si fuera una especie de libro gordo de petete sus ejemplos que ha puesto unos cuantos cogidos por los pelos desde luego no le iban a servir a usted para defender una tesis doctoral sobre

sin embargo se ha olvidado usted de decir que este llamado procés se ha basado durante años en tres premisas que se han convertido en tres mentiras tres premisas básicamente

la primera que iba a tener el inmediato reconocimiento internacional la segunda y que el coste económico iba a ser cero se han demostrado una absoluta falsedad y han sido una de las causantes del fracaso de este procés sería bueno que al menos reconocieran ustedes que se han hecho las cosas un poquito mal

ustedes lo que no pueden pretender perdóname que se lo diga pero lo creo sinceramente es que este parlamento reconozca lo que ningún país del mundo ningún país del mundo

o que es de a cuadros pero si no se lo reconoce nadie eso no sirve para nada y esa es la situación en la que está esa fantasmal república catalana en el limbo jurídico y en el limbo político

un limbo jurídico o un deseo muy legítimo pero que no ha pasado de eso por parte del parlamento catalán

pero desde luego no puede usted pretender que nosotros asumamos como propia lo que es su forma de pensar la suya la de ustedes pero no la nuestra porque en fin de intentos

sabemos demasiado en euskadi y desde luego no estamos dispuestos a repetir aquella fase de la historia que afortunadamente ha pasado ya

y en una ocasión anterior también he repetido que

el diálogo dentro de la legalidad que si no hay

si no existe igualdad de condiciones de derechos políticos de las distintas realidades nacionales no hay solución no hay solución

que la apelación al diálogo dentro de la legalidad

admitir la supremacía de una soberanía sobre la otra cómo se altera eso cómo respondes a un estado que no quiere maniobrar en la dirección del respeto qué alternativa te queda pues no hay otra que

democrática expresada por la ciudadanía en este caso de cataluña o también de euskadi

una nueva legalidad y ahí se ha producido el choque y eso en primera instancia

pero el problema está encima de la mesa mahai gainean dago horregatik

fueron adoptados por el parlament en sesión del pasado veintisiete de octubre el parlamento vasco rechaza cuantas medidas excepcionales de intervención que al amparo del artículo ciento cincuenta y cinco de la constitución española han sido adoptadas por el gobierno del estado

y su capacidad de autogobierno convirtiendo este en una carta otorgada en lugar de un derecho inherente a la nación catalana y por último el parlamento vasco

que corresponde exclusivamente a la sociedad catalana y a su legítima representación institucional determinar su futuro atendiendo a cauces exclusivamente pacíficos y democráticos

si su único argumento para rebatir lo que yo he planteado durante diez minutos

desde luego pocos argumentos le quedan y desde luego no se meta en cuestiones de otro partido porque si entramos a las de los suyos seguro que salen perdiendo

y por otro lado no dude de nuestra apuesta por el derecho a decidir no dude que hemos sido claros en nuestra apuesta del derecho a decidir siempre allá donde lo planteemos pero tenemos nuestra forma de plantearlo que es igual de legítimo porque no es algo patrimonializable nosotros tenemos nuestra opción que eran los referéndums pactados vosotros tenéis un referente

que es cascos azules nosotros tenemos un referente que es quebec

de negociar que es tratar de llegar a acuerdos con un estado para poder sacar adelante la voluntad democrática libremente expresada

política y social del estado al igual que es un proyecto político legítimo la transformación democrática del estado y eso es nuestro proyecto político

y un poso para su proyecto político que supone la negación de la transformación política y social

podéis justifica vuestro proyecto político que lleva durante muchos años reivindicando opción igualmente legítima que es la independencia pero que tampoco se ha materializado por lo tanto tampoco creo que nos podamos poner a comparar ni a dar lecciones de eficacia política

aquí la cuestión y si vamos a cuál es en este momento la situación en euskadi es que hoy en euskadi si nosotros cogemos el euskobarometro en la mano

mira hay casi el doble de personas que prefieren el estatus territorial diferente al actual

hoy en euskadi las personas que optamos por fórmulas de ecosoberania somos el doble

hoy en euskadi es más del sesenta por ciento de la ciudadanía quiere ser consultada por sobre estatus territorial pero a todo esto hay que ofrecer una respuesta

vías para poder canalizar esta voluntad democrática nosotros

por un lado proponemos un nuevo estatuto que explora el máximo las potencialidades del actual marco legal

un pacto de claridad para hacer efectivo el derecho a la ciudadanía a decidir el estatus territorial y además sin ningún riesgo de fractura social

cuál es su opción puesta sobre el papel y marcada sobre objetivos punto por punto y luego

a hablar al señor sémper que ha hecho una pequeña referencia

y sí que me gustaría responder que lo que espanta empresas

en cataluña en euskadi en españa y de forma científicamente contrastada

ustedes incapaces de asumir el pasado

sino que también están ustedes descolocados profundamente descolocados en el presente yo creo que

van a fracasar porque este parlamento no va a cometer este absurdo de reconocer la república de cataluña es un fracaso de bildu del que nos vamos a beneficiar todos

yo creo nosotros creemos y estamos intentando

entre todos intentando construir una convivencia cada vez más fuerte estamos intentando todos dirimir

diferentes sentimientos de pertenencia las diferentes sensibilidades de una manera ordenada de una manera civilizada sin romper la convivencia que es precisamente lo que ustedes han intentado a lo largo de toda su trayectoria política es diametralmente lo contrario nunca se ha esperado a la izquierda abertzale o se les ha esperado pero nunca ha sido posible y nunca ha sido factible en el pasado a que atendieron a esa llamada para defender

se dotan de herramientas para convivir pero que esas herramientas nunca pueden ser

avanzamos y a pesar del inmenso daño que han provocado en esta sociedad avanzamos y hoy el futuro de euskadi es infinitamente infinitamente mejor porque al final su modelo de convivencia es el que no piensa como ustedes fueran del pueblo y este modelo

está siendo desterrado cada vez con más rotundidad

no le puedo aceptar y el señor egibar decía que él observaba de una manera avezada como se está montando el argumento en torno a lo que él decía la pobreza y tal yo solo he montado no he montado ningún argumento he intentado compartir una descripción de la realidad que por otro lado

los datos objetivos de empobrecimiento de la economía catalana derivado del miedo que está provocando que ha provocado todo este dislate en la propia cataluña son de otros objetivos que dos mil cuatrocientos empresas se lo voy a repetir

no es montar un argumento es la realidad de lo que está sucediendo

el domicilio fiscal y por lo tanto vayan a pueda suponer esto un grave perjuicio en la economía y en la recaudación catalana pues es una realidad objetiva que

política se lleva muy mal extraordinariamente mal con la estabilidad

todo esto en cataluña que la convivencia política en cataluña se ha deteriorado de una manera

que la propia convivencia ciudadana que la propia sociedad catalana se ha tensado hasta cotas insospechadas pues creo que también esto es una realidad objetiva que no me estoy inventando

es describir una situación para señalar que es muy malo lo que está sucediendo en cataluña dicho de una manera

europa se creó para derribar las fronteras para que después de la segundo

no nos volviera a suceder de hecho hoy las fronteras no tienen ninguna virtualidad en europa esto es una realidad que va avanzando y a la que no solo nos tenemos que adaptar sino que desde luego nosotros nos queremos adaptar y es una realidad positiva y es una realidad positiva insisto no solo para los partidos políticos o para los políticos haya cada cual lo que opine pero es una realidad objetiva para los

y aquí de lo que se trata es de que tenemos que construir algo juntos no tenemos más remedio

tenemos que ser capaces de construir algo juntos en esta sociedad que como todas las sociedades modernas es una sociedad compleja cada uno es de su padre y de su madre en la que hay gente que viene de una tradición política otros que vienen de otra

que se llama euskadi y tenemos que ser capaces de articular los mecanismos de convivencia que nos permitan reforzar esa convivencia pero no tensarla no romperla no empobrecernos

tengamos un marco jurídico y legal que no otorgue beneficios a uno por ser nacionalista en detrimento de otro que no lo es

y tenemos que ser capaces de articular y de fortalecer la convivencia en base a instituciones sólidas como es esta como es el parlamento vasco como son las diputaciones

que otorgan confianza a los ciudadanos y que son instituciones edificantes por las decisiones que adoptan y por la seriedad y el rigor

y con el que desarrollan su actividad política no como el parlament de cataluña que solo genera incertidumbre y que solo ha generado empobrecimiento y este es nuestro ofrecimiento y esta es la posición del partido popular en euskadi ofrecimiento al entendimiento a la convivencia y a construir un futuro juntos entre diferentes respetando los marcos legales de los que nos hemos dotado y que si no gusta señor egibar hay una solución se cambian pero que mientras no se cambien los respetamos todos

por ser nacionalista no va a tener que respetar la ley muchas gracias eskerrik asko sémper jauna eztabaida

el decreto trece barra dos mil dieciséis de dos de febrero de intervención

del país vasco lo que trata es de regular y de establecer un marco normativo que recoja todas las actuaciones de forma coordinada

en la atención temprana y todas las intervenciones como digo en los niños entre cero y seis años con el objetivo de darles y de proporcionarles

una atención coordinada integral y multidisciplinar

de la interpelación que el desarrollo infantil es algo dinámico

diferentes funciones y esos primeros años son muy importantes porque se adquieren las funciones que tienen que ver con el control postural la autonomía en el desplazamiento comunicación

en ese proceso dinámico de adquisición de todas estas funciones en el desarrollo infantil

factores y que cualquier alteración en estos elementos puede o es susceptible de producir un trastorno

desarrollo estas alteraciones obviamente se pueden producir en cualquier fase

desarrollo y por lo tanto todos somos conscientes de la magnitud y transcendencia

problema esto fue lo que motivó que ya en el año dos mil dieciséis se impulsara una reflexión en el ámbito de la comunidad autónoma del país vasco con objeto

por parte de todas las instituciones implicadas gobierno vasco y las tres diputaciones sobre todo viendo que había una cierta descoordinación y que también

de ellas no era exactamente el mismo

reflexión en el año dos mil doce sí que hay un borrador de decreto pero en ese momento

de varias instituciones de dos diputaciones concretamente no gobernados en ese momento por el partido nacionalista vasco gobernadas por el partido popular y eh bildu pues manifestaron sus recelos ante ese borrador por entender que no quedaban claramente delimitadas

en la prestación de servicios de programas de acciones específicas a los niños entre cero y seis años y por tanto manifestaron sus recelos

en el dos mil dieciséis se aprobó el decreto finalmente con el conjunto de servicios programas y actuaciones que se contemplan en el ámbito de la atención

a seis años desde luego la evidencia científica claramente pone de manifiesto la importancia de actuar en estas edades tempranas para

de lo posible esos trastornos o incluso en algunos casos también prevenirlos de forma absoluta a nuestro entender y así también lo hemos denunciado y puesto de manifiesto en otros ámbitos institucionales

deficiencias como son retrasos en las valoraciones atascos en las listas de espera de acceso a los servicios merma en las intensidades de los tratamientos prescritos por el y tampoco

de las responsabilidades en los ámbitos concretos de sanidad educación y servicios sociales sí que es cierto que tal y como además manifestó la consejera

que más pronto que tarde se establezca ese marco estable de financiación que nosotros reclamábamos en el segundo punto de la moción que permita saber con exactitud

qué financiación o qué gasto corresponde a cada uno de los tres ámbitos competenciales que intervienen o interactúan en la atención a estos niños nosotros con esta iniciativa

intentado paliar o subsanar de alguna

esos fallos que está produciendo la aplicación del decreto creemos que además que hace recientemente hace bueno va a hacer dos años pero se ha aprobado

saber con exactitud después de la aplicación de este decreto en este año y pico dónde están los fallos dónde están las deficiencias y dónde se pueden

del decreto que sean susceptibles de ser mejorados por eso planteamos

importantes dos cuestiones que creo que han quedado claramente

a leer en el que como digo hay un acuerdo unánime por parte de esta cámara hemos llegado a un acuerdo todos los grupos lo cual yo creo que es algo muy positivo y esperemos también que una vez que los grupos hemos respondido con un acuerdo unánime al gobierno vasco al que le ponemos

también responda y desarrolle las actuaciones previstas en este acuerdo que tienen que ver con el propio desarrollo del decreto en vigor como decía para nosotros dos eran las cuestiones importantes que el gobierno vasco asumiera sus obligaciones y competencias en los ámbitos que intervienen en dar la atención a estos niños que presentan trastornos

en las fases correspondientes que ya se prevén en el propio decreto primaria secundaria o terciaria también como quedó aquí claro con las explicaciones de la consejera

la interpelación y por lo tanto que se asuman esas competencias en estos tres ámbitos sanidad educación y servicios sociales y por otra parte nos parecía

que se estableciera un marco estable de financiación para cada uno de estos tres ámbitos con el objeto de que finalmente se pueda garantizar esa atención

referencia el decreto por lo tanto hemos llegado a un acuerdo

algunas propuestas específicas que también

específicamente eh bildu y podemos y por lo tanto yo creo que también

ha quedado en ese sentido bastante completo

el parlamento vasco insta al gobierno vasco en un primer punto a implementar en el marco de

en virtud del decreto trece barra dos mil dieciséis de dos de febrero de intervención integral de atención temprana en la comunidad autónoma del país vasco es decir desarrollar las competencias que le corresponden en virtud de este decreto también ha desarrollar las

sanitarios social y educativo y también en un tercer punto a definir el marco financiero que sea necesaria para asegurar

de cero a seis años y en particular para ofrecer servicios especializados aquellos que requieren

o se encuentran en riesgo o situación de padecerlos

la aprobación de este decreto el distinto desarrollo de las actuaciones por parte de las diferentes instituciones intervinientes

se insta al gobierno vasco a elaborar un itinerario para la implementación del catálogo de títulos estudios y competencias profesionales aprobado por el consejo interinstitucional de atención temprana y en un sexto punto garantizar la capacidad de las familias de elegir centros de atención temprana tal y como se recoge en los principios rectores

a la razón de ser de la iniciativa original a la moción presentada por este grupo que también

a la consejera hace dos jueves exactamente y yo creo que es un acuerdo positivo y esperemos que el gobierno vasco

las medidas que le corresponden para prestar esa atención de calidad a los niños entre cero y seis años besterik gabe eskerrik asko

onartutako mozioa benetan balioetsi nahi dugu en el modelo de atención temprana elaborado en el año dos mil ocho y con el aval de los tres departamentos implicados

sobre una base genética determinada interactúan multiplex factores biológicos psicológicos y sociales

y en cualquier etapa supone un riesgo para el desarrollo del niño

tiene que ver con el valor de la equidad la justicia social y el concepto de bienestar en una sociedad avanzada

la diversidad y la autonomía y posibilitando en último término la mayor participación social dicho esto nos hemos encontrado con una situación institucional que presenta dificultades para brindar de la manera más adecuada en el tiempo y la forma la atención que necesitan

aun reconociendo que existe un entramado de servicios que pueden brindar apoyo especializado lo cierto es que estos no están dando toda la respuesta necesaria

este rico y complejo entramado de servicios programas y actuaciones que sin duda

presenta todavía hoy una disfunción que es necesario solucionar funciona de forma parcelada

y cuando la administración pública falla cuando los servicios no responden como las familias necesitan siempre y digo siempre

y a pagarlas de su bolsillo pero no todas pueden seguro que sabemos de lo que hablo hablo de niñas y niños que acceden a derechos y apoyos que necesitan en función de la capacidad adquisitiva de las personas adultas que los rodean si los sistemas públicos no funcionan en muchos casos acceden en otros casos

así que efectivamente hablar de garantizar la atención temprana es hablar de futuro es hablar de oportunidades de equidad de justicia social pero también

del gobierno vasco es hablar de la cartera de servicios es hablar de competencias de financiación de personas en situación de dependencia y de quien las cuida de sus familias y en muchísimos casos es hablar de las mujeres que hay

encontramos un modelo de atención con servicios y profesionales comprometidos pero en el que se reflejan todos problemas del conjunto del sistema que por activa y por pasiva

y ámbitos de debate problemas en el despliegue de la cartera de servicios desigualdades territoriales

dificultades para asumir con claridad las competencias que le corresponden a cada nivel institucional atención fragmentada solapamiento y duplicidades y en el peor de los casos uno por el otro y la casa sin barrer la falta de liderazgo

sin problemas de fondo son perdón problemas de fondo estructurales problemas que tenemos que abordar para eliminar listas de espera brindar intervención integral y coordinar una intervención que sea de la misma calidad para las niñas o los niños que vivan en barakaldo en irún o en oyón

que es desde luego la prioridad para todas y todos en la infancia el factor tiempo como ya saben es clave para prevenir y revertir trastornos celebramos

que con los aportes de todos los grupos parlamentarios propone medidas de profundidad más ambiciosas e integrales y que nos invitan

fortalecer la coordinación institucional desarrollando protocolos de coordinación y derivación según el decreto tres barra dos mil dieciséis cuestión que está recogida textual en el acuerdo y dotar de los recursos necesarios a los sistemas de salud de educación y servicios sociales para asegurar el acceso

aquellos que presenten trastornos en el desarrollo o estén en riesgo de hacerlo cuestión que consideramos que queda suficientemente recogida en otro de los puntos de la transacción que se presenta además de eso en esta transacción se recoge cuestiones que consideramos imprescindibles y que vienen a dotar calidad y de mayor amplitud los objetivos que se perseguían con la proposición inicial agradecemos a todos los grupos la disponibilidad para llegar a este acuerdo a pesar de las dificultades y demostrando una vez más que somos capaces

o que supone que nos digan que nuestro hijo o nuestra hija que es perfecto tiene un trastorno por déficit de atención hiperactividad o un trastorno del espectro autista nos lo podemos imaginar no imajinatu dezakegu bai agian

dekretu hori ya sabemos que el decreto tiene como objetivo establecer las normas básicas para la organización y coordinación del conjunto de intervenciones en el campo de la atención temprana esas que se desarrollan desde los diferentes servicios

en el que se coordinen adecuadamente las actuaciones que de uno y otro se llevan a cabo guk konpartitzen dugu dekretuaren helburua beharrezkotzat jotzen dugu planteatutako asmoa

kezkak baino esango genuke que lo que pasa con este decreto es lo que en general pasa

en muchos de los temas de ese espacio socio sanitario es que es un pequeño enredo

no lo ponemos nosotros en duda el objetivo que se persigue también es adecuado y nosotras lo compartimos

la atención temprana es todavía un concepto de límites difusos no aclarados por este decreto que se ha integrado muy bien en el discurso político y técnico

en lo que es su construcción teórica y sobre todo en su aplicación técnica y sin resolverlas sale este decreto porque efectivamente el papel lo aguanta todo eso lo sabemos todas yo creo que para que cualquier responsabilidad compartida funcione y se puedan dar esos espacios de coordinación

como objetivo en el decreto se tienen que dar tres claves uno tiene que estar claramente definido qué hace cada cual

saber qué responsabilidades asume cada uno de los sistemas y qué fuerzas pone cada uno de los sistemas para garantizar la atención temprana integral dos tiene que quedar claro

y además tiene que pasar que todos los sistemas intervinientes en la atención temprana se reconozcan y se reconozcan como iguales pero

temprana se da en un marco de relación que es extremadamente desigual y que eso tiene sus efectos en el decreto y en el desarrollo de las actuaciones previstas en el decreto liga ezberdinetan jokatzen dute

eta gaitasuna y está ahí la necesidad de definir un modelo claro de financiación que además nos dijo la sailburu que se estaba trabajando en ello y nosotros consideramos que en lo que

es indiscutible la necesidad de estudiar fórmulas de financiación conjunta entre los tres sistemas entre los tres entre todos luego podíamos

el decreto en cuanto a la organización que hace de lo que es la propia integración en cuanto a lo que son los propios ratios en cuanto a las figuras profesionales que contempla

y hay muchos desequilibrios también hay una especie de popurrí en algunos temas en los que los profesionales de lo social siempre aparecen un poquito

y lo que decía es un enredo es un enredo

con una vocación más pragmática y operativa y eso implica de una manera u otra entrar a desarrollar los elementos que el decreto no ha aclarado sentsu honetan

presidenta vamos a tratar en este punto la moción consecuencia de la interpelación presentada por el partido popular relativa a la atención temprana

temprana en la comunidad autónoma del país vasco estableció el marco normativo en la atención temprana

a la misma tanto en el ámbito educativo en el sanitario y los servicios sociales con la finalidad de garantizar una actuación integral y eficaz

en los tres ámbitos indicados este decreto fue fruto

en el dos mil diez y donde se ponía de manifiesto la necesidad de establecer un modelo coordinado de atención tanto entre el gobierno vasco con las tres diputaciones forales porque se vio que unos y otros tenían una situación diferente

que elaboró un documento el modelo de atención temprana para la comunidad autónoma del país vasco que sirvió de referencia a la comisión técnica interinstitucional

sirvió con posterioridad para la elaboración del decreto trece barra dos mil dieciséis

participaron las tres diputaciones lo que queda claro es que hay que seguir avanzando en mejorar la coordinación entre el gobierno vasco y las tres diputaciones introduciendo las correcciones necesarias

pasos adelante en esta materia tan importante pero hay que destacar también que se han dado pasos desde su aprobación

y más importantes de este decreto es que se amplió la edad de cobertura que hasta ese momento existía de cero tres años a

es un gran avance ya que en estos primeros años de vida el desarrollo

por lo que adquiere una gran importancia detectar lo antes posible trastornos o alteraciones de desarrollo del niño

a una edad temprana y que no tenga consecuencias negativas posteriores en los niños y las niñas afectados al poder ser total o parcialmente corregidos

con trastornos en su desarrollo o en riesgo de poder padecerlos interviniendo tres ámbitos el educativo el sanitario y el de servicios sociales dentro de este decreto trece barra dos mil dieciséis se establece la estructura de coordinación interinstitucional que es fundamental entre los tres ámbitos debiendo de tener en cuenta dentro del mismo el consejo interinstitucional de atención temprana

de atención temprana hay que tener en cuenta además en materia de financiación de los equipos de intervención de atención temprana que se está elaborando por la comisión técnica interinstitucional de atención temprana como han dicho

un estudio de gasto en qué se está incurriendo para

y al educativo que una vez concluido

en cuenta a los efectos oportunos nosotros creemos que es importante contar con ese estudio que

finalice para saber de qué estamos hablando exactamente y qué parte le corresponde dentro de la financiación a cada una de las partes del sistema afectados

la misma detalló las actuaciones efectuadas en el ámbito del gobierno vasco tanto en el ámbito educativo sanitario y de servicios

asumiendo las competencias que le correspondían en materia de atención temprana pero creemos

para avanzar que se está avanzando también en la coordinación entre las distintas instituciones pero que se pueden seguir dando pasos adelante por eso creemos importante el esfuerzo que se hace en la enmienda transaccional

y me alegro que todos los grupos parlamentarios hayamos conseguido poder llegar a un enmienda transaccional unánime

los grupos de la cámara para ir dando más pasos adelante y seguir completando el desarrollo de toda esta normativa no voy a entrar a todos los puntos porque ya se han ido

intervenciones también de los representantes de otros grupos pero sí destacar que dentro de la misma se hace referencia a la necesidad de llevar a cabo los desarrollos necesarios para que se definan claramente se concreten el tramo de edad qué competencias le corresponden

sociales así como también el marco de financiación respectivo de cada uno de ellos y también fortalecer y seguir avanzando en esa coordinación que como he señalado

fundamental entre las distintas instituciones afectadas y desarrollar para ello unos protocolos de coordinación derivados de la aplicación

y por otro lado también me parece importante el punto sexto la de garantizar la capacidad de las familias de elegir el centro de atención temprana tal y como se recoge en los principios rectores y aunque lo establece el artículo seis yo creo que es importante destacarlo también en la enmienda

que es una buena enmienda transaccional y que implica avances y por ello

no se menciona la modificación del reglamento lo cual nos parece

en el que lleva en vigor y también creo que ha sido la postura de todos y de todas las portavoces la que ha facilitado el poder alcanzar el acuerdo el reglamento trece barra dos mil dieciséis ha supuesto un hito importante en la organización y coordinación del conjunto de intervenciones que en campo de la atención temprana se desarrollan

la educación y los servicios sociales con el fin de garantizar un modelo integral y eficaz en el que se coordinen adecuadamente las actuaciones de los tres sistemas mencionados

elementos fundamentales de ordenación de un modelo de intervención en el que se coordinen las actuaciones de los sistemas implicados y por el contrario no lo es el establecimiento de las actuaciones que deben desempeñar cada uno de los sistemas intervinientes la concreción de las mismas es competencia de cada uno de los sistemas que

las respectivas carteras de prestaciones y servicios siempre de acuerdo al ámbito de sus propias competencias mozioaren lehen puntuan eskatzen dena

dicho decreto ha supuesto una mejor organización y coordinación de los sistemas que intervienen en la atención temprana destacando bat arreta goiztiarra zero sei urteko

por lo tanto el decreto ha supuesto avances importantes se ha ampliado el servicio a prestar en atención temprana hasta los seis años cuando antes

ha determinado las competencias de cada uno de los ámbitos que se ven involucrados en la atención temprana establece las funciones adscritas a cada uno de los mismos y aunque todavía la oposición cree que se podría haber concretado más a nosotros nos parece un avance considerable el haber sido capaces de acordar y plasmar

de la administración involucrados asimismo es importante reseñar la labor tanto de la comisión técnica interinstitucional como del consejo interinstitucional de atención temprana por estar los distintos ámbitos administrativos de euskadi representados y por poner en valor el consenso previo alcanzado para llegar hasta la elaboración

hona plazaratzea eta euren garrantzia ematea respecto al reconocimiento de las titulaciones como exponía la consejera artolazabal el pasado veintisiete de octubre

el catálogo de títulos estudios y competencias profesionales que sirven para la acreditación de la cualificación profesional el acuerdo se recogerá en la normativa pertinente

andrea bueno cada uno tendrá las razones para haber suscrito un acuerdo

la presentación de la interpelación y la moción del partido popular fueron el subsanar unas deficiencias que considerábamos que se habían demostrado claramente con la vigencia de este decreto o la puesta en marcha de este decreto y sobre todo en línea

mantuvo en todo el proceso de reflexión previo anteriormente a la aprobación de este decreto en el año

dos aspectos muy claros que son lo que tiene que ver con las competencias que tiene el gobierno vasco en la prestación

de la atención temprana a los niños y niñas entre cero y seis años en los ámbitos de sanidad educación y servicios sociales

había que de alguna forma subsanar o clarificar una cierta indefinición que había en relación a estos tres ámbitos

en la atención temprana a los niños entre esta edad y por otra parte el tema de la financiación se está estudiando sobre el tema de la financiación

estable de financiación también en estos tres ámbitos sanidad educación y servicios sociales

los objetivos y los fines de este decreto en relación con la prestación de una atención coordinada integral multidisciplinar a los niños entre esta edad besterik gabe eskerrik asko y agradecer a los grupos
la firma del acuerdo eskerrik asko garrido andrea

mozioa josé ramón becerra carollo elkarrekin podemos taldeko legebiltzarkideak aurkeztua

egun on guztioi cuando hace quince días interpele a la consejera de trabajo sobre general electric podría haber interpelado también a la consejera de desarrollo económico o al lehendakari

la deberíamos responder la debería responder cualquier miembro del gobierno cualquier miembro de esta sociedad qué hacer cuando una empresa se deslocaliza si quien la deslocaliza es una multinacional tan poderosa como general electric

que siemens gamesa también va a deslocalizar plantas que también va a despedir trabajadores y trabajadoras podríamos hablar de las causas de estas deslocalizaciones pero hoy toca hablar de las consecuencias consecuencias en primer lugar para las personas por el empleo directo que se destruye para la sociedad por el empleo indirecto

del país por la actividad económica inducida que deja de haber por parte de la industria hacia los servicios y toca hacer frente al problema

desde nuestro grupo somos conscientes de las limitaciones que tiene un territorio pequeño como euskadi y un gobierno regional como el gobierno vasco

globalizado donde se globalizan los capitales y al mismo tiempo se globaliza el hambre se globaliza las guerras se globaliza la pobreza y

y esto va de eso precisamente de globalizar el trabajo precario porque lo que busca la deslocalización es exclusivamente incrementar beneficios a costa de abaratar la mano de obra durante años hemos visto como empresas de euskadi se iban a china

a méxico a india pero no acaban ahí china a día de hoy se está deslocalizando en filipinas la india en pakistán méxico en centro américa

siempre habrá alguien más pobre que lo haga por menos dinero siempre

tendremos que empezar a concluir en primer lugar en este debate que está bien competir en un mercado global pero que es imposible competir

no podemos competir en eso china tiene un salario mínimo interprofesional de

la india de cuarenta y uno el salario medio de un licenciado licenciada en la india donde se va deslocalizar la ingeniería

euros al mes si cobran ciento ochenta están bien pagados

no podemos competir con eso ni podemos ni debemos esta es una lucha difícil y desigual

como he dicho antes pero también hay reconocer que no cabe rendirse no cabe bajar los brazos

generalmente siempre van un paso por delante del resto y nos dan ejemplo

por eso es importante que la primera batalla que demos en esto sea la batalla ideológica la batalla del relato porque no es cierto no es cierto que las empresas se vayan de euskadi porque tienen dificultades económicas y quiero traer aquí las declaraciones que hizo arantza tapia el verano pasado cuando se supo de esta deslocalización

reestructuración tras haber transmitido hace tiempo que la planta inaugurada hace poco más de un año no estaba respondiendo a las expectativas previas

cuáles eran esas expectativas previas y yo se lo diré general electric ganó

cincuenta millónes de euros cincuenta millónes de euros

que no subió prácticamente nada entre dos mil diez y dos mil dieciséis no subió ni un uno por ciento anual por lo tanto si ganaba dinero en una época con los mismos costes cuál es la razón real de que se deslocalice se lo voy a decir también alstom alstom

tenía un margen de beneficio medio del diez por ciento

alstom era menos competitivo obviamente el pez grande se comió al pez chico como le dije el otro día

le resultó que de su margen de beneficio de dieciséis pasaba al quince por ciento

y lo siguiente fue el plan de despido de seis mil quinientos personas en toda europa solamente porque había bajado el margen de beneficio de un dieciséis por ciento a un quince por ciento y el plan es que con esas seis mil quinientos personas lo suben de un quince por ciento a un dieciocho por ciento

el objetivo es aumentar el beneficio

exclusivamente y esas seis mil quinientos personas que se vayan a la calle

porque no cumplen las expectativas de beneficio de la empresa

pero decía la señora tapia ellos hicieron esa apuesta pero el mercado quizás no ha respondido a esas expectativas y quizás haya más elementos que analizar en profundidad

cuáles son las razones reales por las que se va una empresa de euskadi la causa real es que la empresa una vez que tomó esa decisión eliminó la carga de trabajo

era la de grenoble en francia duplicaron el coste de personal de forma artificial y entre dos mil quince y dos mil dieciséis vendieron por valor de cuarenta y siete millónes y compraron por valor de noventa y cuatro millónes compraron el doble de lo que vendieron para qué para tener pérdidas y lo consiguieron entre dos mil quince y dos mil dieciséis

solo hay que hacer la suma y la resta es un plan premeditado para cerrar la planta de forma artificial para incrementar el beneficio el margen neto

porque esto que he referido aquí en españa y en euskadi es ilegal es ilegal es ilegal

los jueces lo ha dicho la jurisprudencia en este caso voy a

que dijo claramente que si bien es entendible desde el punto de vista estrictamente subjetivo productivo empresarial la deslocalización no lo es desde el punto de visto objetivo de la legislación laboral y de la responsabilidad social a la que las empresas se deben

de obtención de un mayor beneficio y no en pérdidas que dificulten su sostenibilidad futura no tenía perdidas general electric cuando se decidió que se iba a cerrar las ha tenido después

y es obligación de este país y de todas las instituciones de este país

y la ley se cumpla no vale que se cumpla solamente en cataluña no vale que se cumpla solamente cuando están los desahucios también

sus plantas y en esta batalla en esta batalla también hay una siguiente batalla que es la batalla administrativa porque el ere en el que ahora mismo está

es esencial y donde el informe de esa inspección de trabajo es un informe preceptivo con valor probatorio para que los tribunales puedan

a la planta de poder sobrevivir porque posiblemente el proceso de consultas del ere no va a dar su resultado y por lo tanto la única esperanza que le va a quedar es que el gobierno de este país y las instituciones de este país

una cierta unidad con la plantilla y con aquellas comarcas que se van a ver perjudicadas por el cierre fíjese cuando general electric anunció sus planes a principios de dos mil dieciséis se planteaban como he dicho seis mil quinientos despidos mil setecientos en alemania

setecientos sesenta en francia y casi seiscientos en el reino unido mucho más que lo que se plantean aquí esta semana siemens

cuál es la mecánica de todo esto la gran compañía multinacional

se mueven y tratan de negociar con la multinacional las condiciones para mantener la actividad es una subasta es una subasta y se cierran antes las plantas que primero arrojen la toalla

los territorios y los países que muestren menos interés o decisión en mantenerlos cuando a principios de dos mil dieciséis se supo la deslocalización que planteaba general electric en francia

dijo textualmente vigilaremos para que general electric mantenga su compromiso

de crearlos eso dijo emmanuel macron qué dijo la consejera tapia se lo voy a leer unas empresas van muy bien y otras se encuentran en dificultades

eso es lo que dijo eso es lo que ha dicho también el lehendakari

no estamos protegiendo a nuestra industria señores y señoras no la estamos protegiendo

a costa de lo que sea por eso hay dos cosas que se precisan fundamentales para poder hacer frente a las multinacionales y en ningún caso con garantía de éxito la primera es

la unidad de la plantilla con la sociedad y con las instituciones que representan esta sociedad y la segunda es la firmeza firmeza para que se cumpla la ley

y firmeza para negociar con discreción las salidas y alternativas viables que puede haber como parlamento no tenemos la solución a los problemas de la plantilla

pero sí tenemos voz y voto y usemos esta voz y este voto con unidad y con firmeza para dejar claro que general electric ortuella no se cierra muchas gracias

muchas gracias señora presidenta yo no voy a repetir porque casi suscribimos todo lo que ha dicho el señor becerra pero sí quiero matizar algunas cosas en primer lugar decir que retiramos nuestra enmienda porque estamos de acuerdo con la transaccional a la que hemos llegado todos los grupos de esta cámara

es noticia esta semana porque recorta la mitad del dividendo porque se está desplomando en bolsa un quince por ciento y todo proviene de actuaciones

vamos a dejarlo así a nivel global y a nivel mundial en lo que a nosotros nos afecta que es a la planta de ortuella y cuando hablamos de deslocalizaciones de empresas las empresas se deslocalizan

y nunca me han planteado que el problema de la

o los salarios de los trabajadores es más

que ese no ha sido el problema nunca y qué echo en falta en

un marco más competitivo y estable para todas las empresas un marco más competitivo y estable

porque en los últimos tres años se han deslocalizado del país vasco unas ciento cuarenta empresas y ese marco que atraiga más empresas

porque si alguien lo que decide es que se traslada porque puede ganar mucho más dinero en otro sitio y no porque la planta sea rentable suficientemente rentable

que no hay marco estable que eso lo pueda sostener

o sí pero lo que nosotros echamos en falta en este gobierno es que

no sea una prioridad y cuando hablamos de reformas fiscales nos referimos a eso cuando hablamos de infraestructuras nos referimos a eso

es evidente que este gobierno no es el accionista principal de general electric ni de ninguna otra empresa y menos si es multinacional

de tener un marco competitivo y estable para todas las empresas

pero la mayoría de las empresas no son y de los empresarios no lo son

en función del beneficio que necesiten obtener los fondos de pensiones que son sus accionistas creo que se han cargado hace escaso tiempo

también hemos leído por ahí en la prensa un fenómeno y luego plantean que hay que cerrar plantas por todo el mundo

digamos a seguir o a favorecer ni siquiera su implantación aquí ahora bien está aquí y la

esta y todas así como es obligación del gobierno vasco intentar atraer más empresas las empresas no se atraen diciendo quiero que vengan

se atraen poniendo condiciones para que vengan y repito no son los sueldos de los trabajadores el problema en el país vasco

yo nunca le he oído a confebask plantear eso ni a ningún empresario plantear eso

pero yo les he oído hablar de la factura eléctrica yo les he oído hablar

yo les he oído hablar de infraestructura de falta de conexiones con sitios importantes y esa es la obligación de este gobierno desde luego en este caso yo creo que es mucho más obligación de este gobierno

exactamente por la estricta legalidad de ese ere por qué

pues aquí hay cosas que no cuadran pero que no le cuadran a cualquiera ni me cuadran a mí ni le pueden cuadran al gobierno porque una empresa en plena crisis económica

de repente está en pérdidas eso evidentemente en fin no parece muy lógico las empresas que daban beneficios

luego dan más y el gobierno vasco aquí sí tiene una labor que hacer en ese ere y el gobierno vasco tiene que velar porque se cumpla la legalidad

que veo complicada que puedan salir pero por lo menos que sepan no solo nuestro grupo creo que todos los grupos del parlamento que

y que intentaremos que el gobierno vasco haga todos los esfuerzos posibles para que esta empresa mantenga los puestos de trabajo

formal o una cuestión obligada sino que también es reconocimiento sincero

de conflicto a estos trabajadores ingenieros delineantes a estas personas que trabajan por sacar adelante sus empresas en el día a día cuando se les sitúa en la tesitura de tener que pelear por el futuro de sus puestos de trabajo y de sus empresas se les lanza a una dinámica en la que tienen que ser además también economistas abogados abogadas tienen que saber un poco de todo tienen que construir una alternativa de futuro y realmente

llevan en huelga indefinida desde el nueve de septiembre llevan desde esa fecha incluso antes en movilización permanente y también están llevando adelante unas negociaciones durísimas

para intentar apurar todas las opciones de futuro benetan eskerrik asko zuen borrokari esker zuen lanari esker besteak beste

también tenemos que luchar contra las deslocalizaciones por supuesto el señor becerra ha hecho alusión a lo que está suponiendo este problema donde siempre nos vamos a encontrar siempre

siempre nos vamos a encontrar alguien que cobre menos impuestos el problema es que en esa carrera inagotable por más salarios más bajos impuestos más bajos no podemos competir porque nuestro modelo industrial no se basa en eso me viene a la mente

se presentaban para hacer un trabajo las cuadrillas de trabajadores y los patrones hacían una subasta y se la adjudicaban al que se lo ofreciera nosotros no podemos entrar a una subasta de derechos a la baja ni a una subasta de impuestos a la baja ni a una subasta de medidas de regulación medioambiental a la baja nosotros tenemos que desarrollar un modelo que ofrezca otra cosa a las empresas que ofrezca un completo ecosistema industrial gente formada efectivamente buenas comunicaciones

avanzada y no subastar a la baja nuestros derechos y nuestros impuestos porque es una carrera que no tiene límite

social o ecológico movámonos con esa presteza dejemos de perseguir

un daño inmenso en la recaudación fiscal de los gobiernos y en otros casos mediante el dumping regulemos precisamente normativas más severas para impedir no solo el dumping económico sino también el dumping social y salarial quería hacer también mención a una cuestión que se ha quedado desgraciadamente fuera del acuerdo que es la alusión a dónde está

una zona minera que junto con la margen izquierda y la

creo que componen lo que para algunos se podría llamar el lejano oeste

abandonado a su suerte desde hace años en el cual se ha dado un proceso intensísimo de desindustrialización

ya euskal herria bildu propuso en el año dos mil quince que se hiciera una ponencia parlamentaria para estudiar su situación esperemos que en el marco de esa ponencia que fue aceptada y en la cual hemos de reconocer que todos los grupos han participado con entusiasmo esperemos que se culminen los trabajos con propuestas reales materiales concretas medibles y tasadas económicamente para hacer un plan de reactivación integral de estas comarcas basado

garantiza un tejido productivo fuerte y unos indicadores socio económicos saludables también hubiéramos querido hacer una mención

una ley contra las deslocalizaciones porque nosotros y nosotras

llevamos años reivindicando la necesidad de que exista una ley que en caso de deslocalización la impida adopte medidas de sanción contra las empresas que quieran realizar esa deslocalización especulativa llevamos años proponiéndolo en este parlamento la última en el marco del plan de industrialización y desgraciadamente no pudo ser el día que se inauguró la planta de

estaban representantes del gobierno en la foto y yo no la he exhibido hoy esa foto como algo criticable porque me parece muy bien efectivamente cuando se da una buena noticia en términos

hay que estar en la foto de la inauguración y nos parece bien que el gobierno esté en la foto de la inauguración

y hay otros sitios donde no se sacan fotos y ahí también hay que estar y en esta pelea que están llevando adelante

los gobiernos y en este caso el gobierno vasco y no tiene que estar como intermediador

del derecho al mantenimiento de los puestos de trabajo y tiene que estar a favor como parte activa y comprometida con el mantenimiento les esperamos también en esa foto y les esperamos en esta lucha y mientras tanto ánimo pelear hasta el final porque se puede conseguir general electric ortuella aurrera

haberos podido saludar antes pero no hemos tenido la oportunidad de concertar una reunión debatimos hoy una moción que su autor

en otra titulación se deriva de una interpelación que se realizó a la consejera de trabajo y de justicia en el pasado pleno de control una interpelación en el que el señor becerra ponía de manifiesto como ha hecho también hoy y ha reiterado después eh bildu la situación de los trabajadores de la planta de ortuella que se enfrentan a la decisión de la multinacional general electric

trabajadores que son conscientes según sus propias declaraciones de que la empresa ha decidido

china e india y por una cuestión de costes

que en europa y quiero dejar claro a este respecto una cuestión que ya manifestó la consejera maría jesús san josé pero que tengo la sensación de que no se escuchó

los socialistas cuestionamos no compartimos rechazamos la deslocalización de centros productivos basada en la simple conveniencia empresarial de obtener un mayor beneficio nuestro convencimiento no está con esas empresas sino aquellas empresas que se ubican en nuestro país

a la sociedad no está en las empresas que buscan ese enriquecimiento rápido y esa desubicación cuando no se cumplen las expectativas que ellos tienen a corto plazo espero

porque usted dice es imposible competir con mano de obra barata es imposible pero es que además no queremos

en costes salariales reducidos lo que queremos es competir con trabajadores de alta cualificación

con ese tipo de inversión productiva no queremos competir con sueldos bajos

donde tendríamos que empezar a trabajar verdad por la conquista de derechos sociales de los trabajadores para que no exista esa posibilidad de competencia que le quede tan claro

en asegurar que en la tramitación del ere que ha sido presentado por la empresa se cumpla con todos los requisitos y garantías que exige el actual marco legal un marco

que va a informar no solo sobre el cumplimiento de las formalidades que vienen determinadas en el estatuto de los trabajadores sino que también va a valorar la suficiencia o adecuación de las mismas en orden a justificar si las medidas empresariales pretendidas y cualquier otra cuestión que el inspector determine son correctas

elkarrekin podemos lo haya sugerido en la interpelación a la consejera sino porque el gobierno vasco tiene muy claro cuál es el papel que debe desarrollar y que desarrolla la inspección de trabajo

que tal y como se puso de manifiesto por la consejera en el año dos mil doce se operó una reforma normativa

que produjo una modificación importante relevante en esta materia y de la que no fuimos protagonistas los socialistas y que precisamente afecta

en estos procedimientos de despido colectivo señor becerra se ha pasado y lo sabe usted de un procedimiento que estaba sometido a una autorización de la autoridad laboral

de traslado a la empresa de observación de la misma pero le voy a contar una cosa porque he visto que usted ha estado muy ducho en buscar sentencias de tribunales superiores de justicia y nos ha venido a decir que no tenemos la solución que tenemos voz y voto pero que igual

el gobierno vasco en un momento determinado creyó que se podía hacer más y lo hizo

intentan que pase desapercibido o que no existió y puso pie en pared

del gobierno de rajoy pero dentro de sus competencias lógicamente eso que nos han ido ustedes hablar de explotar las competencias que tenemos de creernos el autogobierno que tiene

buscó en su momento fueron medidas alternativas a lo que nos venía de fuera ahí estaba el tema del medicamentazo pero también con la reforma laboral quisimos hacer algo

y para reclamar unidad que podemos tenemos un congreso de los diputados que está capacitado para derogar esa reforma laboral en este aspecto concreto y dar a los trabajadores la oportunidad de que sea la administración

y luego concluiremos en ello la única vía que se les ha dejado es acudir a los tribunales pero lo que yo le digo señor becerra el gobierno socialista qué hizo pues dictó una instrucción desde la dirección de trabajo la instrucción dos barra dos mil doce

y dirigía instrucciones concretas a los jefes territoriales para que desplegaran toda su actividad investigadora año dos mil doce para qué y por qué

y aunque carezca de efecto vinculante para los jueces que después tendrán que examinar el expediente y es el único camino que les queda a los trabajadores si no consiguen un acuerdo con la empresa es que el alcance de ese informe es cierto no resulte irrelevante en ese procedimiento sino que tiene un valor probatorio que puede defender

precisamente el objetivo de aquella instrucción que aquel gobierno socialista dictó para que las inspecciones de trabajo no fueran meros fedatarios públicos

algo que difícilmente puede conseguirse si no se entra examinar el contenido del ere presentado de los documentos aportados de la realidad

difícilmente se podría argumentar si existe fraude o dolo en lo presentado si no podemos analizar las causas

que si se aprecia dolo o fraude se pondrá de manifiesto en el informe y se actuará en consecuencia

pues diga bueno argumentos del partido socialista del grupo socialista no estos argumentos míos son copiados literalmente

supremo sala de lo contencioso de hace exactamente ahora un año

la recurrió y el tribunal superior de justicia del país vasco la tumbó pero persistimos

esto se podía hacer y que esto salvaguardaba lo que significaba cumplir en un control de los expedientes

o no lo crea existe un compromiso de los socialistas y de este gobierno con la garantía de los derechos de los trabajadores antes de que ustedes

a su intervención y yo no sé si es que usted no estuvo muy receptivo o parece que el tono tiene que ser más alto para parecer que dices más pero se dice lo mismo en un tono que en otro en su intervención usted pedía cuando terminada la intervención en el pleno pasado usted nos pedía

a la administración y al gobierno para que estos gigantes no nos borraran en el mapa pero yo le voy a pedir también

se lo he dicho antes no aquí se la voy a pedir en el congreso de los diputados tuvieron vértigo a apoyar un gobierno socialista que podía haber hecho cuestiones distintas desde entonces

allí donde podemos porque con el boletín oficial se modifican muchas de las condiciones de los y las trabajadoras de este país y de todo el estado en ese sentido

para que los trabajadores no se quedaran solamente en encontrarnos detrás de ellos sino en tener un instrumento eficaz para evitar como usted dice el barrido de los gigantes

y sabe perfectamente que llevamos dos días trabajando para que esa unidad se produzca hoy en esta cámara y sabe usted también que el compromiso de los socialistas ha estado detrás de alcanzar este acuerdo y nos vamos a solidarizar con la plantilla ellos lo saben no son palabras vacías nos solidarizamos contra la situación hemos sufrido eso

y conozco perfectamente qué significa el proceso de desindustrialización y no todo tiene lógica porque yo tampoco soy capaz de explicar por qué en este momento la naval con carga de trabajo es cuando está en una de las peores situaciones hay cosas que a veces la lógica no las explica pero nos vamos a rechazar también y lo hemos dicho todos la deslocalización de actividades basadas en esa búsqueda exclusiva de un mayor beneficio vamos a instar a que

por el gobierno vasco adopte las medidas contra las deslocalizaciones desde las competencias que esta comunidad autónoma puede tener porque vamos a pedir a la inspección y así se lo dijo también la consejera de trabajo que actúe con toda su capacidad

de este expediente y vamos a pedir al gobierno que realice todos los esfuerzos necesarios para promover un acuerdo entre los trabajadores y la empresa que persiga el mantenimiento de los puestos de trabajo de la planta de ortuella no nos hagamos trampas es a ellos a los que les corresponde

no va a haber solución en las consultas bueno no se puede tirar la toalla hasta el último minuto y uno más después

para animarles para apoyarles y para impulsarles espero

que esta vez les haya quedado claro cuál es el compromiso socialista
con la defensa de los derechos de los trabajadores muchas gracias eskerrik asko castelo anderea euzko abertzaleak aiartza jauna zurea da hitza

su laboriosidad persiguiendo el acuerdo también es de justicia porque es muy importante para todos este acuerdo en esta cámara

de los grupos o de los diferentes grupos hacia el acuerdo pero no puedo olvidar hoy

objeto de esta moción voy a ser crítico con usted si tuviese que sintetizar esta su interpelación del pasado viernes

cuál es el grado de compromiso de su departamento dirigido a la consejera de trabajo y justicia y cuál es el grado de compromiso del gobierno vasco antes de entrar a valorar compromisos seguramente mi valoración del grado del compromiso del gobierno diferirá de la suya tengo que constatar que para usted la clave es esa

en concreto debemos tener y nos decía le cito un compromiso como país

vayamos todos a una la verdad es que suena bien compromiso y todos a una unidad de acción

de los que también se acordaba la señora castelo

bufetes de abogados y equipos pensando en cómo cerrar plantas en cómo llevarse la producción para incrementar sus beneficios a mí así de entrada

solo con compromiso usted se indigna o se indignó con la consejera

a mi juicio lo suyo sonaba aparentemente bien pero lo de la consejera me suena mejor en una situación de este tipo

más cuando según sus propias palabras tienen bufetes de abogados y equipos pensando es decir utilizan el derecho

es el entorno donde la parte más débil en el caso de un expediente de regulación de empleo tiene más garantías de evitar el intento de fraude eso intentó explicarle y que su función la de su departamento la función de la inspección

se cometa dolo coacción o abuso la consejera no le hizo una lectura de un anodino y trivial procedimiento administrativo le dio las claves de un sistema donde la parte más vulnerable

esas garantías me parecen debilitadas muy debilitadas pero nunca renunciaría a ellas

el estatuto de los trabajadores en su artículo cincuenta y uno despido colectivo

febrero de dos mil doce la reforma laboral supuso

de la actuación de la autoridad laboral en los despidos colectivos como ya se ha recordado aquí a partir de esa reforma ya no es necesaria su autorización la autorización de la autoridad laboral para llevar a cabo un despido colectivo esa es la situación

me gustaría otra normativa mucho más garantista sin duda sí

es la que tenemos garantías el informe de la inspección conforme al real decreto

coincido con usted en esto señor becerra es pieza clave de garantía puede ser muy efectista en un discurso

causas económicas fraudulentas fraudulentas fraudulentas es muy efectista terminar el discurso así pero lo realmente esencial

la verdadera existencia de esa vulneración eso es lo esencial estoy convencido estoy convencido que esta herramienta el informe

que en esta herramienta si existe ese fraude el rigor del informe

lo determinará tengo toda la confianza en el celo y en la profesionalidad de la inspección de esos trabajadores públicos

objetivos nos decía usted mi objetivo mi objetivo que la planta siga aquí y siga abierta y siga siendo viable y el nuestro y el nuestro de acuerdo y que además yo le diría que permanezca esta y todas las demás

proyectos que no sean cortoplazistas y buscando el rápido enriquecimiento

este gobierno apuesta por las empresas que se implican social y económicamente con el territorio y este gobierno reconoce que la gran

se implican de esa manera compromiso me gustaría volver al compromiso

y ahora sí que me gustaría valorar un poco compromisos el compromiso de la consejera el compromiso del gobierno

va más allá ejerciendo su labor de mediación nos decía la propia consejera con independencia al informe de la inspección el gobierno el gobierno está actuando coordinado el departamento de trabajo y justicia el departamento de desarrollo económico todo el gobierno esto nos recuerda

también todos sabemos que hay reuniones sistemáticas de empresa y representantes de trabajadores con los dos departamentos casi podríamos decir que están

yo sé que tienen sus teléfonos unos los de otros y se llaman constantemente

y a usted también le consta señor becerra y al señor

fotos también le consta por eso no entiendo y me dirijo a usted que evoque ese todos juntos en el compromiso

diga que el departamento de desarrollo económico no habla con la plantilla que solo habla con la empresa además de incierto es injusto y no ayuda a nadie también me parece grave e incongruente con su argumentación

cuando dijo que la consejera tapia no tiene intención de analizar nada en profundidad porque la consejera según usted la consejera tapia

neoliberal a esto solo le voy a contestar con una leve sonrisa y diciéndole que

no por la auto aplicación del calificativo sino por ser congruente con la naturaleza de las cosas y con las conductas que a una determinada persona

de verdad bienvenido hoy señor becerra a la congruencia con la naturaleza de las cosas

solidaridad e impulso para la plantilla de general electric de ortuella para las trabajadoras y trabajadores y sus familias eskerrik asko

el viernes pasado de haber usado un tono inadecuado con la consejera

porque es cierto que la consejera rechazó la deslocalización de empresas como socialista que es pero también mencionó que había que ceñirse al procedimiento

y yo creo que no es suficiente el procedimiento no lo es suficiente porque antes de iniciarse ese procedimiento de ere la plantilla

presentó un informe a la inspección de trabajo denunciando todas las irregularidades que yo he puesto de manifiesto en mis dos discursos todas y cada una de ellas y la inspección de trabajo todavía no ha contestado nada a la plantilla al respecto cuatro meses después por lo tanto era obligación mía como representante de mi grupo interpelar a la consejera de por qué nos ceñimos solamente al procedimiento

tiene la información la inspección de trabajo desde hace tiempo y podría haber hecho algo más la inspección de trabajo respondió que no iba a hacer nada hasta que no tuviera el ere encima de la mesa

estoy de acuerdo con el señor aiartza en que es esencial determinar la existencia de vulneración claro pero para determinar esa existencia se lo acabo de decir a la señora castelo hay que investigar si no investigamos

uno de estos días le va a quedar a la inspección de trabajo quince días para investigar ya lo dije en la interpelación qué van a investigar en quince días señor aiartza si no han investigado en los cuatro meses anteriores

eso es compromiso claro que van a tener que determinar los tribunales y coincido con ustedes además en que la reforma laboral nos aboca a ello

el gobierno siendo cierto que no puede hacer nada para impedir el ere sí puede poner a trabajar los medios de los que dispone y eso

y yo he leído aquí la frase de lo que dijo macron cuando se enteró de los cierres y la que dijo arantxa tapia dónde ve usted más compromiso dónde ve usted más compromiso eso es compromiso claro que todo el mundo queremos que la fábrica siga abierta claro que sí pero para eso es necesario involucrarse y no voy a utilizar este debate para

estar unidos y unidas junto a los trabajadores y trabajadoras coincido con el señor damborenea en que los salarios no son el problema

no lo son pueden ser más altos que en otros sitios pero también el valor añadido en la industria vasca es mayor ojalá algún día

también en que no todo el capital que se atrae a euskadi es positivo no todo el capital que se atrae a euskadi es positivo y que hay capitales y capitales

con eso seguramente tendremos un panorama mucho más despejado

en dos mil dieciséis la consejera de desarrollo económico dijo textualmente la fusión siemens gamesa es una oportunidad para la industria vasca para que no se pierda el arraigo y el compromiso

nos veremos dentro de menos tiempo de lo que piensan ustedes aquí defendiendo que no se cierre una planta de gamesa porque

que toda inversión no es igual y cuando alguien busca de inversor a un fondo de pensiones americano que evidentemente está obligado a ganar un quince o un veinte por ciento de sus inversiones para pagar las pensiones de los trabajadores que están ahí

o sea que supongo que también estamos de acuerdo en eso yo no pensaba intervenir en esta segunda

modelo global y la unión europea es un modelo global y además queremos estar y es bueno estar

lo que plantea el señor trump en estados unidos y en el resto del mundo y nosotros ahí no estamos de acuerdo

y la subasta de impuestos vamos a ver la fiscalidad de las empresas es

de las fórmulas de mayor competencia

fíjese que lleva treinta años intentando armonizar el impuesto de sociedades y no se consigue y no me hable de paraísos fiscales fuera porque qué es paraíso fiscal irlanda

los beneficios que obtienen fuera pagan cero pagan cero pero es que le voy a decir algo más

el que sostiene el gasto público es el impuesto con el que menos se recauda con los que se sostiene todo es con el irpf y con el iva y eso se mantiene y se incrementa teniendo más trabajadores

con sueldos buenos y estables y eso cómo se consigue con inversiones reales y siendo competitivos y creando más puestos de trabajo que los crean las empresas

no los va a crear el gobierno vasco y le voy a poner un ejemplo ustedes gobiernan en navarra

le voy a decir la frase que tienen colgada en la página web oficial del gobierno de navarra en la reforma fiscal que aprobaron el año pasado literalmente dice los tipos de las pymes siguen por debajo del estado y la cav y la cav somos nosotros por qué pone en su reforma fiscal que son más bajos

pero por qué en la página oficial del gobierno de navarra dice los tenemos más bajos porque está compitiendo ustedes su partido su gobierno compite con esta comunidad autónoma en la atracción de empresas entonces no me haga el discurso de que esto de la competencia fiscal y la subasta no vale

con gusto dedicaría toda mi intervención a responderle pero bueno vamos a centrarnos un poco en el tema que nos ocupa pero no me resisto a hacer un par de apreciaciones sobre esta última intervención

pero aunque en proporción el impuesto de sociedades sea una parte menor del cómputo global de lo que se recauda

y que a día de hoy aporta la mitad de lo que ese mismo impuesto aportaba hace ocho años es el impuesto de sociedades precisamente nosotros no vamos a competir aportando a las empresas que paguen menos impuestos

que les aporte otro tipo de valor que también es imprescindible

derechos laborales respeto al medioambiente y también unos ingresos fiscales suficientes no solo para garantizar servicios a la ciudadanía sino también para promover

y de alto contenido tecnológico se decía que se dicen a la ligera una serie de cosas como fraude y demás no yo al principio de mi intervención

se tiene que ver convertidos ahora en una especie de economistas que hagan propuestas y pongan encima de la mesa todo tipo de estudios de viabilidad pero es que lo están haciendo ellos sus abogados sus consultores los sindicatos y cuando se habla de denuncias señor becerra decía creo el decía el día veinticuatro creo que el veintitrés de junio

una denuncia sólida y esa denuncia no recibe el tratamiento que debiera y los trabajadores no están conforme con ello y luego se presenta el ere después y se quiere subsumir una cosa con la otra y los trabajadores no están de acuerdo con ese tratamiento que se ha dado y hasta el día de hoy siguen sin estar de acuerdo por tanto aquí no hay denuncias demagógicas o denuncias fáciles sino que aquí hay estudios con datos con números con contabilidades

la tesis de lo que aquí se está viniendo a defender y es que estas pérdidas son inducidas y que se enmarcan dentro de un proyecto global de hacer desaparecer de europa una parte de la empresa

y en este caso que afecta al cierre de la planta de ortuella

castelo no sé si alguna vez le han dicho que usted tiene un acordar que parece un discrepar porque claro si venimos aquí hacer un punto en el que se supone que estamos todos de acuerdo creo que ha venido más a subrayar las diferencias y además

porque los que hemos intervenido con anterioridad no hemos querido cargar las tintas contra el resto de los grupos precisamente porque habíamos llegado a un acuerdo que como todos los acuerdos supone dejarnos pelos en la gatera

pero bueno por lo menos lo que hemos planteado es que este gobierno asuma como propio el reto de tratar de defender

la continuidad de la empresa y no se sitúe en un papel de mero arbitraje hace poco en

el de orduña donde quieren poner o querían poner o servir el comedor de la escuela desde un edificio que estaba en la calle de enfrente y en la administración les ponía tramites porque no cumplían con los reglamentos de sanidad y solo había que cruzar una calle es un tema sobre el que aquí

pues había un funcionario que les puso todas las trabas del mundo y no se pudo no se pudo hasta que vino otro y si se pudo y por eso estuvimos hablando del tema pues aquí hay que hacer para que se pueda y al final quizás no se pueda

que salve a todas las empresas ni siquiera a todas las empresas salvables

es que haga todo lo que esté en su mano y no se limite a decir bueno pues aquí tengo una cuestión que la trato con una frialdad técnica absoluta no hay que comprometerse y nadie le está pidiendo cuando nos dicen

de la unión europea mire nuestro grupo está a favor de que en determinados casos se practique

pero evidentemente es algo que no puede ser sistemático y aplicado en todos los momento y por tanto si décimos que se haga una ley contra la deslocalización

no sea papel mojado pero es que ustedes parece que se pone siempre como decía antes de la herida y me da pena y decía que nosotros también nos hemos dejado pelos en la gatera

un compromiso expreso por parte de toda esta cámara y en particular de los partidos que sustentan al gobierno con un proceso activo de reindustrialización y yo sé que está

que se acuerde eso en el marco de esa comisión pero a mí me gustaría que desde ya se mandará ese mensaje a estas comarcas porque realmente

a la naval en la margen izquierda y a cel en enkaterri que son tres de las grandes empresas punteras que aún sobreviven

en estas comarcas y que hoy se encuentran en la situación en la que se encuentra por tanto me hubiera gustado eso me hubiera gustado también ser más exigente con el gobierno y me hubiera gustado otra serie de cosas pero bueno prefería ceder

y a los que están negociando hasta el último momento con la empresa puedan irse con la sensación de que al menos

estamos haciendo todos los esfuerzos que nos corresponden para darles apoyo en una situación con la que están pasando eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

bueno voy a empezar agradeciéndole públicamente también

porque sí nos consideramos o sí nos sentimos ofendidos en su intervención en el pleno pasado además

no he bajado el diario de sesiones porque en el último momento

que más allá de las normas que más allá de las normas se iba a poner todo de su parte para poder dar una solución en esta situación

cumplirá fielmente con lo que la ley dice que tiene que hacer y ya le he dicho yo antes por si no le quedó claro qué es lo que creemos los socialistas porque así lo escribimos en su momento qué es lo que tiene que hacer la inspección de trabajo aun a pesar de la reforma laboral entonces no sé quién se pone la venda antes de le herida es decir

a clarificar la postura de los socialistas porque me dio la sensación de que de la interpelación y de algunas de las cuestiones que aquí se decían no quedaba

que la señora castelo explique cuál es la postura del grupo socialista porque deja en evidencia que no son los únicos que defienden los intereses de los trabajadores y las trabajadoras y que lo que nos importa la comarca de ezkerraldea de meatzaldea

pues hombre eso es una cuestión que cada uno cuando la dice debería de mirárselo cada uno se ofende cuando quiere yo creo que no hay que poner en dudas señor becerra y esté usted con la

el departamento de trabajo ha puesto en marcha todos los mecanismos que tiene a su disposición no solo de la inspección sino también de la mediación y de la intermediación para llegar al fondo de esta cuestión para supervisar y ese informe cumplirá fielmente

revisará de una forma exhaustiva los condicionantes y las cuestiones

sustanciado este ere pero sí que es cierto que aun a pesar de cuál sea el informe o de que sea el mejor informe que la inspección de trabajo pudiera realizar para los trabajadores yo también

y ese es el objetivo hoy de este compromiso unánime en el que todos

en la gatera las ha dejado podemos las ha dejado el partido nacionalista vasco

en el que lo que tenemos que trasladar a esto aquí es mandar un mensaje claro

y el mensaje tiene que ser claro el parlamento vasco en esta cuestión

y no de la empresa cuestionamos la actitud de la empresa

el procedimiento todo lo que nos permita el marco jurídico que tenemos para estar en esa posición

a que hasta el último minuto y más allá sigan intentando acuerdo que garantice el mantenimiento

para sus puestos de trabajo muchas gracias eskerrik asko castelo andrea

hablábamos del texto transado si me hubiesen dicho hoy

que íbamos a firmar un texto de esta amplitud y que lo íbamos a votar todos

yo por lo menos no me lo creería de inicio tendría

amplitud del texto y claridad reconozco como dice

y sí me gustaría que llegase a toda la sociedad y fundamentalmente a esas personas

con lo cual lo del día del acuerdo yo también voy a renunciar a alguna cuestión por el día del acuerdo porque creo que el acuerdo puede hacer impulso fuera de esta cámara sin ninguna duda sí le voy hacer dos apreciaciones una más técnica

conozco la implicación como decía el señor casanova de las trabajadoras y los trabajadores la implicación incluso en cuestiones tremendamente técnicas en defensa de sus puestos de trabajo

pero en cualquier caso y reconociéndolo en cualquier caso me parece en cierta manera no justo o peligroso prejuzgar el trabajo de la inspección usted prejuzga el trabajo de la inspección utiliza un plazo

o no sabe si se está trabajando de esa manera pero utiliza una comparativa de plazo para prejuzgar el trabajo de la inspección dejemos trabajar a la inspección dejemos trabajar a la inspección esta cuestión más técnica y luego una cuestión

con compromiso que nos ha traído

las declaraciones de macron y de la consejera tapia realmente yo tampoco he visto en esas declaraciones esa gran diferencia que usted dice en cualquier caso

compromiso y decíamos

compromiso y herramientas yo no le conozco a macron le conozco a la consejera tapia y el compromiso

para mí y creo que para usted también pero en el ámbito de las herramientas son sustancialmente diferentes las que tiene la señora tapia

y usted está reconociendo esa realidad en la que se mueven

estos dos agentes porque lo está reconociendo lo está reconociendo porque coincide con nosotros en la crítica a la reforma laboral

tiene otras herramientas nosotros tenemos las que tenemos

en nuestra comunidad son evitables esta es una frase contundente y categórica que corresponde

de osalan para mi grupo ante una frase de esta contundencia y que compartimos

nos cabe una conclusión no se están haciendo las políticas correctas ni los esfuerzos suficientes o necesarios

el problema de la siniestralidad laboral y de las muertes en el trabajo esta afirmación que hacía el director de osalan lo hacía en el transcurso de las valoraciones respecto a la siniestralidad laboral del año pasado del año dos mil dieciséis donde

de trabajo había un aumento de más del cuatro por ciento respecto al año anterior y donde también aumentaban los accidentes con consecuencia de muerte

sabiendo que esta lacra en buena medida es evitable en lo que llevamos de año dos mil diecisiete sabemos ya que los accidentes de trabajo están aumentando de nuevo un cuatro por ciento y también

de manera más notoria con más de un cinco por ciento por lo tanto nosotros creemos que las políticas que se hacen no son las correctas y por eso hacíamos una enmienda

señalar dos cosas uno intentando ir a la raíz o decir explicar por qué creemos que siguen sucediendo

accidentes y dos intentar señalar en qué dirección creemos

las políticas ese cambio de rumbo ante una cuestión que no es absoluto coyuntural y no nos vamos a agarrar a los datos de los

porque es verdad que aquí hay años peores y hay años mejores si cogemos todo el histórico es una hoja de sierra pero lo cierto es que los accidentes de trabajo son una constante en nuestras empresas y que no puede ser que las trabajadoras y los trabajadores

y la vida precisamente para ir hacer aquello que necesitan

que es trabajar por eso nosotros creemos y señalamos que una iniciativa que salga de este parlamento hay que decir

nosotros creemos que los accidentes de trabajo tienen su raíz precisamente en las precarias condiciones generales de trabajo que tenemos que si bien son consecuencia del sistema capitalista en el que vivimos

de la patronal sobre el conjunto de las trabajadoras y trabajadores si bien esto es cierto también es verdad que las legislaciones que aprobamos

sean más o menos acusadas y en este momento

últimas reformas laborales esas relaciones de poder están absolutamente desequilibradas si hace cien años triunfaba el lema todo el poder para los trabajadores hoy lo que tenemos es todo el poder

y eso es lo que ha pasado en los últimos años y por eso no es casual que las incidencias de accidentes laborales en el conjunto del estado hayan sufrido

laborales por lo tanto nosotros pensamos que es una cuestión política de fondo una cuestión ideológica pero que puede ser también abordada con medidas concretas nosotros pensamos que hay que señalar esto porque es importante al margen de decir

que hay que hacer más prevención que en eso estaremos de acuerdo todos los grupos de la cámara sin lugar a dudas creemos que es importante que hay que decir o si estamos de acuerdo

la lógica de las actuales relaciones laborales y la lógica de nuestro actual modelo de trabajo que es la lógica de que los intereses

de la salud y la seguridad en el trabajo y los intereses económicos de las empresas son importantes otra cosa es que podamos discutir quién se tiene que llevar los beneficios que yo ahí seguro no estaría de acuerdo con la mayoría de ustedes

pero nunca pueden estar por encima de la salud y la seguridad de las y los trabajadores y nosotros décimos que eso pasa hoy en día la prevención está muy bien la concienciación está muy bien nosotros no nos opondremos a que haya más

pero la realidad concreta en las empresas es que no es suficiente porque la mayoría de las y los trabajadores están concienciados e incluso

una acción que pueda poner en riesgo su salud no lo hacen porque no estén concienciados lo hacen porque la dinámica concreta en las empresas

y porque necesitan en ocasiones arriesgar su salud o su seguridad porque tienen que anteponer no perder sus puestos de trabajo y esa lógica hay que revertirla y hoy en día las políticas que se hacen no van en contra

de esa lógica nosotros señalamos algunas cuestiones o medidas concretas

que hay que realizar para cambiar las políticas en el sentido que les estoy señalando hablamos de empleo de calidad pero hablamos de empleo de calidad

frases manidas vacías nosotros hablamos de primero desde lo público hay una responsabilidad primero que el empleo público sea de calidad porque es ejemplo y es tractor y que el empleo privado

pública tiene que ser un empleo de calidad y hoy en día eso no pasa

donde empresas privadas trabajan para otras empresas que al final trabaja para la administración

no tengan las medidas adecuadas que a veces no sepan ni a qué empresa pertenece el capataz que les está dando las instrucciones ese día en el trabajo y eso repercute

y hablamos también además del empleo de calidad del control del control porque la prevención también es control

que ser previo y ahí es donde nosotros también y en la transacción que hemos llegado con eh bildu hablamos de vincular las ayudas económicas a las empresas al cumplimiento estricto de la legalidad y hablamos también nosotros proponemos hablar más de las multas y suele ser feo que tener que hacer de policía malo y hablar de las multas

y que nos dan desde osalan y en el año pasado año dos mil dieciséis se pusieron multas

por el valor de un millón setecientos y pico mil euros

y cuarenta muertos la media nos da que el gasto que hacen las empresas en multas es

de trabajo nuestra salud y nuestra seguridad vale mucho más que eso y hablamos como decía por lo tanto de medidas disuasorias creemos que importante hacer hincapié en las medidas disuasorias y es cierto que el departamento ha hecho algunas cosas

sino de cambiar la orientación de las políticas y hoy en día es muy fácil montar una empresa pirata que no cumpla prácticamente ninguna medida de seguridad porque para que la pillen en la mayoría de los casos tiene que pasar que los trabajadores denuncien y sabemos

por miedo a ser despedidos por lo tanto nosotros planteamos una iniciativa que finalmente hemos

donde señalamos la raíz de los problemas y donde señalamos posibles soluciones

partido popular partido socialista y partido nacionalista vasco donde básicamente lo que dicen es sigamos haciendo

haciendo nosotros décimos que hay que cambiar el rumbo por lo tanto no nos vale que ante los datos que tenemos que dicen que esta lacra continua evitable digamos que tenemos que seguir haciendo no vale con seguir haciendo hay que cambiar el rumbo de las políticas destinadas a acabar con la mayoría de los accidentes de trabajo eskerrik asko

gracias señora presidenta buenas tardes

bien pues vamos a hablar de los accidentes laborales que es lo que nos trae hoy aquí y una de las cuestiones más importantes que con relación a la

que indicar es la que dieron los sindicatos cuando comparecieron

de cambiar la filosofía con relación a los accidentes laborales que creo que se está cambiando

accidente laboral no es admisible que no pueden ser consustanciales los accidentes al trabajo porque

de todos y por ello también evitar la siniestralidad laboral debe ser una tarea de todos la responsabilidad de velar por la seguridad de los trabajadores

pero es una tarea como digo que incumbe a todos a la ciudadanía a los sindicatos a la administración todos juegan todos jugamos un papel como también igual que los accidentes es tarea de todos limitar los riesgos psicosociales es decir aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral

están directamente relacionadas con la organización con el contenido del trabajo con la realización de la tarea y que

y también al desarrollo del trabajo y lo que tenemos que preguntar porque tenemos que seguir avanzando porque no partimos de cero es verdad que los datos luego los daré están ahí pero hay que seguir avanzando y que lo que tenemos que preguntarnos partiendo de esta filosofía es si

este es un reto que se ha propuesto la unión europea para el ámbito de la seguridad vial para dos mil cincuenta partiendo de un primer reto que es reducir al cincuenta por ciento los accidentes actuales para el año dos mil veinte y esta iniciativa basada

y es la que ha revolucionado la seguridad vial a nivel mundial y la visión se basaba en tres pilares considerar inaceptable toda pérdida de vidas humanas aceptar el error humano y en tercer lugar hacer especial hincapié

una de las cuestiones que yo quiero plantear y que se plantean en europa en este momento es si este modelo es exportable a la seguridad y a la salud en el trabajo y hay iniciativas en este sentido en el ámbito europeo así por ejemplo el instituto finlandés de seguridad ocupacional ha creado el zero accident forum un lugar de encuentro que está fundamentado en el aprendizaje mutuo en el que las organizaciones

en otros lugares de trabajo gozando de la oportunidad de aprender de esas buenas prácticas a nivel internacional

con la siniestralidad partiendo de la base de que cualquier accidente es evitable y muchas organizaciones han adoptado esa filosofía han utilizado incluso ese eslogan como una marca registrada y como elemento en el que una organización

las cosas se hacen bien en prevención a nuestro juicio esa es la filosofía

adecuada pero nos tenemos que preguntar si es alcanzable si realmente podemos llegar al año dos mil cincuenta igual que en seguridad vial en seguridad laboral al cero accidente pues creo que entre todos tenemos que poner los medios para conseguirlo a mí sí me parece importante decir los datos yo los datos que voy a decir son

que señala que en el primer semestre se han registrado dieciocho mil cuatrocientos nuevos accidentes de trabajo con baja

de esos accidentes de trabajo los primeros seis meses quince mil quinientos treinta y dos se han producido en la jornada de trabajo y mil novecientos treinta y cuatro en itinere es decir en el camino al trabajo o de vuelta a casa y en estos seis primeros meses

han fallecido en accidentes producidos en la jornada laboral uno menos

también uno menos que el semestre del año pasado y con relación a las enfermedades profesionales según datos de osalan en el año dos mil dieciséis se dieron dos mil nueve partes de enfermedades profesionales

respecto del año dos mil quince aquí se ha hablado de cuáles son las causas de esos accidentes es verdad como decía que cualquier cifra un solo accidente

es verdad que se han ido reduciendo los datos con dientes de sierra pero como se ha dicho también aquí es verdad que no

en algunas veces con algunos intervinientes que no se ha hecho nada y eso no es así osalan yo creo que ha venido trabajando en esta cuestión se ha comentado aquí

desde otros ámbitos se considera que es la recuperación económica y el incremento de la actividad económica el que ha hecho que haya más actividad y por lo tanto más accidentes laborales

por los inspectores de trabajo son en los mismos sectores en los que vuelven a aflorar estos accidentes de trabajo y vuelven a reiterarse los mismos incumplimientos de la normativa

que además de las condiciones de calidad en el empleo tiene que ver con la no asunción de la normativa de prevención de riesgos laborales normas que se aprobaron en mil novecientos noventa y cinco pero que tanto en tiempos de bonanza económica como en época de vacas flacas no se acaban de cumplir

que desde las instituciones y desde los agentes sociales por lo tanto se debe de insistir en concienciar y en promover

y concienciar a empresas y trabajadores en el cumplimiento de esta normativa de prevención porque el hecho insoslayable es que se repite ad eternum es el mismo tipo de accidentes en españa y en euskadi por lo tanto eso sí que nos

que una verdadera cultura preventiva no se acaba de implantar en nuestro país

se debe incrementar el control y la sanción y las sanciones del poder público pero que también no se puede prescindir de la prevención la prevención con letras mayúsculas que debiera de estar entre las prioridades no solo

de las pequeñas y medianas empresas de todos en definitiva es imprescindible como digo que las empresas asuman las obligaciones relativas a las condiciones de seguridad en el lugar de trabajo en las medidas de protección del personal el mantenimiento del buen estado y de equipos de trabajo en la realización de la evaluación de riesgos en la formación e información a sus trabajadores

estrictamente la normativa laboral con el fin de impulsar empleos de calidad pero también creemos necesario una implicación de los trabajadores

y los poderes públicos tenemos que velar porque esas denuncias

porque redunda en beneficio de todos por ello

se debe insistir en esa apuesta por políticas públicas adecuadas para la promoción y fomento de las medidas preventivas y por supuesto también del control y la vigilancia de los incumplimientos por parte de la inspección

a veces oye cosas en esta cámara que pareciera que los trabajadores de osalan no están cumpliendo su trabajo que no se hacen

sean necesarias más actuaciones pero lo cierto es que los funcionarios están trabajando como digo que sean necesarias más probablemente en ese sentido

en la que digo que hay que seguir implementando porque según nos informó la consejera cuando nos presentó el presupuesto para este año dos mil dieciocho va un aumento precisamente

nosotros también estamos de acuerdo y es verdad que hay otra iniciativa con respecto a este tema y que también lo debatiremos que las instituciones públicas deben de ser ejemplares que deben dar ejemplo y cumplir de forma modélica todo lo referido

laboral para evitar situaciones injustas y de inseguridad yo creo que eso es algo consustancial en las administraciones públicas pero en este sentido también es algo que se viene haciendo también es algo que está incluido en esa enmienda en seguir cumpliendo ese protocolo del dos mil diez

y las diputaciones creo en suma que prevenir la siniestralidad laboral es una tarea de todos creo que debemos de insistir en la prevención porque creo que es fundamental y también la inspección y la sanción cuando las medidas

a los otros dos grupos por la enmienda a la que hemos llegado y que yo creo

que la seguridad laboral no es solo un derecho a la salud sino que debe ser estratégico para la empresa sin embargo durante la larga crisis padecida ha sido una de las grandes paganas

en la responsabilidad que nos compete a las instituciones lo que debemos es poner instrumentos

reclamamos y conseguimos la transferencia de la inspección de trabajo y al asumir la responsabilidad de esta área del actual gobierno

no solo reforzando la labor de la inspección sino reforzando el personal dedicado a combatir la inseguridad es un compromiso neto por parte de los

un camino que recorrer de lo que falta es de lo que habla la iniciativa que debatimos pero discrepamos en las soluciones que se nos plantean

en prevención es una obligación del empresario es una decisión que no puede tomar el trabajador en ningún caso eso es cierto pero se debe concebir la seguridad no solo como una mera obligación que lo es sino como un elemento de calidad

al trabajador le corresponde también como he indicado en otras ocasiones utilizar los equipos participar en la formación cumplir los procedimientos de trabajo establecidos pero en ningún caso puede tomar la decisión de invertir en prevención

compartida con derechos y obligaciones de ambas partes y en la que cada uno de los agentes debe ejercer de manera responsable el cometido que le corresponde apostar por la prevención es la inversión más segura para una empresa

evitables y si se evitan se pueden evitar también muchos accidentes de trabajo para mejorar en seguridad es importante invertir en seguridad realizar

preventivas hacer un seguimiento periódico de las mismas es decir

además también de esas obligaciones porque no basta con cumplirlas si luego las dejas ahí como si estuvieran de adorno y no las cumples efectivamente y realmente

porque la inversión consigue mejorar la eficacia y productividad de las empresas como ha señalado también recientemente la consejera maría jesús san josé un trabajo de calidad debe ser seguro y es un factor de competitividad invertir en seguridad

en esa competitividad es importante no solo contar con un contrato estable y con un sueldo digno también tenemos que trabajar de una forma segura sabemos que el riesgo cero es muy difícil de conseguir pero hay que seguir trabajando diariamente para en las empresas la siniestralidad laboral existente sin embargo las empresas existe una mayor sensibilización

ley de prevención de riesgos laborales y las estadísticas nos demuestran con los datos que se han obtenido que se ha reducido a la mitad

de esos accidentes laborales y es cierto que en el dos mil dieciséis el índice de incidencia era de cuarenta y uno coma setenta y siete

es evidente que se han reducido pero evidentemente

están mejorando de una forma lenta y mientras exista como ya se ha dicho

hay que seguir trabajando para seguir reduciendo las mismas los socialistas vascos creemos en un empleo de calidad seguro y

en esa prevención sin olvidar la formación por parte de los empresarios que es de vital importancia también

de riesgos laborales porque desde luego lo que reduce la siniestralidad laboral independientemente de las condiciones de los contratos que también influyen si son precarios o pueden influir pero lo que más influye es que ese modelo

anteriormente preventivo real y efectivo que garantice la seguridad en la salud de todo el personal que trabaja en la empresa pero también como también se ha indicado

de los grupos que han intervenido con anterioridad hay que realizar controles de ese cumplimiento esos controles son importantes y en asesoramiento y apoyo técnico lo realiza

se viene realizando desde osalan pero también

de trabajo una labor fundamental en el cumplimiento de la seguridad y la salud laboral siendo la inspección de trabajo el único cuerpo que tiene la facultad al final sancionadora de paralización de petición de recargo

que en este caso no tiene osalan pero y por eso

recientemente la consejera de trabajo y justicia

que se han venido realizando campañas de control de contratos a tiempo parcial y temporales dirigidas a reducir la precariedad laboral que siempre va en beneficio de la reducción de accidentes así como también de seguridad y salud laboral y en estos momentos en el ámbito de los recursos humanos con los que contamos

de la inspección con treinta y siete inspectores y diecisiete subinspectores de y seguridad social que durante el año dos mil diecisiete se han incorporado diez inspectores de trabajo nuevos y con lo cual la plantilla que tenemos ahora mismo si contamos también con el

es de treinta y ocho inspectores y que además se va a incorporar

en una ope que está ahora mismo llevándose a cabo celebrándose dentro del año dos mil dieciocho se incorporará y además seis plazas más de un cuerpo nuevo que se crea que no existía antes

de riesgos laborales hasta ahora como he dicho solo existían los subinspectores de empleo y seguridad social este cuerpo se crea nuevo y se incorporan seis se van a

el año que viene que van a tener competencias exclusivas en materia de seguridad y salud laboral con lo cual al efectuar todas sus actividades y toda su actuación en este ámbito

en materias o en actuaciones dirigidas a poder reducir la siniestralidad laboral y por tanto lógicamente también con competencias

la inspección de trabajo con lo cual tenemos en este momento el número máximo de inspectores de trabajo que se ha tenido desde la transferencia de la inspección y además

hemos conseguido en este último año el mayor incremento

en la plantilla que se ha producido en los últimos treinta años

de trabajo aquí en esta comunidad autónoma vasca con lo cual los datos son positivos y además vamos a seguir avanzando como ya he indicado en la ampliación y en el refuerzo de más personas siete personas más para poder actuar en materia de prevención de riesgos laborales para el año que viene con lo cual las cifras son positivas que se refuerzan los recursos humanos pues se van a conseguir muchísimas más actuaciones muchísimo más control en esta materia y siempre va a repercutir positivamente en ese ámbito por eso nosotros creemos que

dirigida precisamente o dirige su enfoque a lo más importante que es precisamente la necesidad de ese aumento de esos medios personales y materiales para poder incrementar campañas de prevención de riesgos laborales pero también ponemos hincapié

a los empresarios al cumplimiento de toda la legislación en materia de seguridad y salud laboral y eso no es baladí porque es a ellos como he indicado

invertir en medios para en prevención de riesgos laborales y por último también se incluye

en el ámbito de la obra pública para que continúe haciendo efectivo

infraestructuras promovidas por las administraciones públicas del país vasco que se firmó ya en el dos de junio del dos mil diez que

diputaciones y que tiene cuenta con un grupo de trabajo que se reúne periódicamente con unos

desde el año dos mil diez que es bastante importante y a donde se llevan cualquier sanción cualquier actuación y se puede también programar actuaciones de inspección y de control dentro de la obra pública específicas

desde el año dos mil diez y que es bastante importante y que ha venido haciendo

muy serio y muy importante de toda la actuación que se hace exclusivamente en el ámbito

del resto de las obras de construcción que puede existir por lo tanto yo creo que hace referencia a cuestiones importantes y

satisfechos por la enmienda transaccional a la que hemos llegado el grupo socialista el grupo nacionalista vasco y el grupo popular recogiendo los puntos que he señalado

que realizó esta afirmación en la interpelación a la consejera de trabajo y justicia

coincido con este planteamiento que hizo el señor urruzuno

otamendi pero sí que tengo que constatar que el discurso de aquella interpelación fue sensiblemente diferente al suyo de hoy y yo no lo voy a obviar

cómo se abordó esta cuestión en aquel momento cómo lo abordó el señor urruzuno nos explicó el contexto nos hizo

y fue llenando un paquete y cerró ese paquete con un lazo va llenando el paquete básicamente con alguna falsedad

que es el gobierno vasco no asume su cuota de responsabilidad hay inacción del gobierno vasco

alguna falsedad referida fundamentalmente a la postura del partido nacionalista vasco en la reforma laboral

una cosa que me llamó también bastante la atención no considero que esto sea

pero referir lo destinado a salud a salud laboral

lo que hizo los catorce millónes de euros entre los sesenta y ocho mil millónes de pib realmente no entiendo

pero bueno y lo que más me interesa el apartado de las medias verdades y quería centrarme en un par de ejemplos

en este ámbito nosotros damos importancia a esta injusticia usted señor

sin ningún rigor usted utiliza a los afectados por el amianto

en ese planteamiento cuándo se infectaron qué prevención de la exposición se hace en este momento cuáles son los esfuerzos que se están haciendo en el ámbito de la vigilancia en la salud

cómo intentamos muchos incluida su coalición corregir la obligada compensación a los afectados y afectadas a pesar de la inacción del estado

se introdujeron esos datos con el suficiente rigor otra cuestión más a mi juicio más centrada

debatimos es el tratamiento de otras estadísticas de las estadísticas ese incremento de accidentes laborales que da título a esta iniciativa los datos de siniestralidad hay un descenso realmente importante en las últimas décadas ya se ha comentado

en el año dos mil pasamos de cincuenta mil accidentes con baja al

ya nos ha explicado la señora sánchez como se ha reducido a la mitad el índice

al cuarenta y uno coma cuarenta y siete un descenso a la mitad en quince años pero efectivamente con dientes de sierra que también lo comentaba la señora llanos y que están recogidos y que se reconocen pero la lectura que se hace en aquel momento solamente pone el foco

una media verdad una media verdad y eso esta cuestión referida a los datos cuantitativos

la labor de osalan durante el pasado ejercicio

las y los profesionales de osalan y me alegra que la señora llanos también haya hecho esta referencia han investigado todos todos

los accidentes de trabajo mortales los muy graves los graves los múltiples y las enfermedades

esa es una base de datos en lo cuantitativo en lo cualitativo perdón increíble esta batalla se gana partiendo

potenciando fuentes y sistemas de información fiables y potentes que faciliten las funciones preventivas y de promoción de la salud no se gana con medias verdades

yo estoy seguro que están preocupados y sensibilizados por esta cuestión estoy seguro y el gobierno es evidente que también

un solo accidente y se ha repetido mucho este concepto y es fundamental seguir repitiéndolo un solo accidente ya es mucho

pero hay que utilizar premisas ciertas y a mi juicio se hace en aquel momento una descripción tan alejada

que no es creíble la realidad además no necesita eso porque la realidad siempre va a ser dura porque no hay un número

porque no hay números hay personas y una persona fallecida ya es mucho al igual que afirmaba la consejera en su interpelación nosotros también creemos en el hecho en el derecho de todas y todos los trabajadores a volver al trabajo en las mismas condiciones

también creemos firmemente en nuestro derecho a llegar a nuestra jubilación al finalizar nuestra vida laboral sin secuelas en nuestra salud y frente aquel lazo del que hablaba inicialmente de no asunción de responsabilidad

mi análisis es diferente nosotros podemos constatar autentica implicación implicación unida a responsabilidad implicación con planificación e implicación con acción podemos ver estas prioridades en la acción del gobierno en el plan de gestión

y yo destacaría cuatro cuatro puntos la necesidad de seguir impulsando la cultura de la prevención de los riesgos laborales es decir la importancia de llevar estos asuntos más allá del ámbito laboral más allá de los centros de trabajo que toda la sociedad sea consciente de su importancia

esta es la cuestión nuclear y voy a hacer referencia a la comisión

y con alguna asociación empresarial que también pasó y hablábamos de esto de la cultura de la prevención lo que hoy

o mejor dicho lo que hace unos años y utilizábamos el símil utilizó algún sindicato el símil de la conducción la velocidad etcétera

ajustándonos un poco al tema de prevención lo que hace unos años era una cuestión digámoslo así hasta cierto punto extraña ponerse el cinturón me han echado una multa por no llevar puesto el cinturón fíjate que faena cultura de la prevención hoy se sienta

aita o de su ama una cría o un crío de diez años y le dice ama el cinturón antes de arrancar cultura de la prevención

en el ámbito laboral hay que seguir promoviendo la investigación sobre el impacto en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras de las nuevas tecnologías la prevención cuatro punto cero los cambios de la forma de trabajo nos obligan a ello la automatización colaborativos etcétera hay que atender con especial análisis o énfasis

las actividades ocupaciones y colectivos con mayores índices de siniestralidad usted también lo ha apuntado y con mayores índices de enfermedad profesiones las pymes autónomos el sector primario la subcontratación y los colectivos con necesidades especiales

y solo lo conseguiremos solamente conseguiremos esto avanzar en esto con el compromiso de todas y de todos

por ello se sigue intensificando desde osalan la coordinación entre los órganos del

en el tema de la investigación de accidentes la colaboración con otras entidades públicas hacemos una referencia en nuestra enmienda a esa cuestión con las diputaciones

yo he hecho una pregunta en esas comparecencias a las que usted hacía referencia señora

por qué algunos que deberían estar en ese órgano no están con todo lo que tienen que aportar con todo lo que tienen que aportar en esta materia

moción decían nos decía usted no se preguntaran a qué viene ahora esta moción a mí me ha sonado un poco a excusatio non petita pero en cualquier caso me parece bien porque siempre es adecuado avanzar

la siniestralidad laboral y aunque hemos pasado por unas comparecencias y vamos a otras comparecencias seguro que esos agentes que vienen a esas comparecencias

aportaciones que trasladarnos que serán creativas

la petición de creación de seis nuevas plazas

no ha habido mucho debate en una cuestión que me parece que es importantísima claro todo el mundo décimos nosotros incluidos alguna serie de obviedades como la preocupación

decimos frases todos nosotros incluidos como que ni un accidente de trabajo es tolerable y es verdad que

también es verdad que los accidentes graves y los accidentes

son evitables yo comparto la opinión del director de osalan en ese sentido

por lo tanto no basta con expresiones que vamos a compartir todos porque habría que ser un verdadero animal para no compartir ese tipo de expresiones claro

es que décimos en las iniciativas sobre lo que hay que hacer y ahí es donde están las diferencias que quizás no se llevan hoy pues a no llegar a un acuerdo

en las cosas que proponíamos no nos ha dicho en qué cosas no estaba de acuerdo está bien porque uno se siente ahí hasta más cómodo cuando no te critican las cosas que has propuesto y

pero cuando nosotros planteamos una serie de cuestiones concretas en la transacción

qué no estamos de acuerdo y a nosotros nos parece o a mí me parece tengo la sensación después del debate que sobre todo se habla desde el partido popular partido socialista y partido nacionalista vasco sobre todo se ha hablado no digo que exclusivamente pero sobre todo se ha hablado de algo a lo que yo me he referido antes bueno prevención

etcétera pero no se habla de qué mercado de trabajo tenemos que yo en mi interior intervención he intentado explicar que para nosotros la raíz del problema está en el tipo de mercado de trabajo que tenemos

y en la correlación de fuerzas que en nuestra opinión o en la relación de poder que en nuestra opinión hay entre dos clases sociales en nuestro país y en tantos otros países y que eso incide en las condiciones de trabajo y por lo tanto finalmente en la siniestralidad laboral y por eso nosotros pensamos que hay que abordarlo desde ahí

una vez más a decir qué malas serán las reformas laborales y además a decirle al psoe que efectivamente la suya tampoco nos gustó no

de que esas reformas laborales son las que inciden en cómo está en este momento esa situación

desequilibrada entre patronales y las organizaciones representativas de los trabajadores y que eso tiene una repercusión directa a la siniestralidad laboral bien por lo tanto nosotros queríamos ir o explicar cuál era la raíz del problema en nuestra opinión y plantear cuestiones concretas que creemos que hay que abordar

lo que finalmente se va a aprobar que no es que sea

pero que básicamente lo que dice es que se siga haciendo lo que se está haciendo hasta ahora efectivamente con algunos incrementos claro quién no va a estar de acuerdo en que invirtamos más

pero lo cierto es que no es solo invertir más sino cambiar el tipo de políticas que se hacen y por eso yo hacía referencia por ejemplo también al escaso control que hay

sino porque realmente no se persigue el fraude en materia laboral se persigue muy escuetamente y es verdad ahora vamos a tener más inspectores de trabajo

es que no estaba muy alto es que el listón estaba por los suelos yo no he estado nunca en una cámara como esta

fue enterarme del número de inspectores que teníamos yo no sabía el número de inspectores que había en la comunidad autónoma

que la ponías muchas veces desde el sindicato porque como decía antes la mayoría de las y los trabajadores no se atreven a denunciar y por eso no es suficiente como ha hecho algún interviniente o alguna interviniente aludir

no pueden denunciar en la actual correlación que hay entre patronos y trabajadores y por eso nosotros hincapié a eso que hay que ir a la raíz del problema y por eso yo creo o mi opinión personal a lo que ha dicho la señora llanos sobre si es trasladable las políticas en materia de seguridad vial sin haberlo reflexionado a fondo yo creo que no

en seguridad vial no hay una correlación de fuerzas entre dos clases de la que surgen unas condiciones de trabajo que nos llevan
a mayor siniestralidad laboral simplemente eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

señor hernández claro que nos podríamos poner aquí a hablar de los distintos modelos económicos laborales

sobre eso puede estar muy bien pero aquí el motivo de la

los accidentes laborales sobre los que además como se ha dicho aquí están hablando distintos comparecientes usted hablaba de la temporalidad y yo le voy a dar datos

público estatal en el conjunto de españa durante el primer semestre de dos mil diecisiete más de trescientos cuarenta y seis mil contratos

ello supone un veintiuno coma dos por ciento más que el año anterior y el setenta y tres

indefinidos y del empleo que se está recuperando el noventa y tres por ciento del que se recupera se recupera a tiempo completo no a tiempo parcial y contratos de un mes que a veces se dijo en la comisión hoy aquí no ha salido pero en la comisión sí se dijo

de los contratos y si nos vamos con datos en euskadi pues se valora que en este año dos mil diecisiete se crearán

y según el consejo de relaciones laborales la contratación indefinida ha subido un catorce coma cuatro por ciento muy por encima de la temporal

por ciento con relación a cuestiones que ustedes planteaban

a cero accidentes yo creo que ese debe de ser el objetivo porque decía la señora otamendi yo creo que

ha entrado en una contradicción ella misma porque por una parte le decía a la señora sánchez que no había accidentes inevitables

que los accidentes son evitables porque lo que ocurre es que cuando hay un accidente no se ha cumplido la normativa de prevención y la normativa laboral establecida luego señora otamendi o son evitables o porque eso decía que un esguince puede haber pero es que igual eso no es un accidente laboral

con un incumplimiento una inobservancia de las normas de seguridad

con lo cual es verdad que se puso por parte de algunos de los sindicatos que vinieron a comparecer a la comisión se ponía

a la reclamación de un marco propio de relaciones laborales a cambiar

pero señor hernández también se hacía referencia a lo que se está haciendo también se hacía referencia a lo que se está haciendo también se venía a decir que se aumentase la inspección también se venía a decir

se va a hacer el año que viene que era parte de nuestra enmienda es decir no venía a decir nada de lo que se está haciendo no vale para nada y cambiémoslo todo no lo que venía a decir es

de las denuncias yo si usted va a los datos de osalan desde luego denuncias hay y unas cuantas

claro que hay que animar a que como en todo los incumplimientos que se producen esas denuncias

aumente y que por parte de los poderes públicos estará en dar los medios suficientes para que esos incumplimientos puedan denunciarse para que

haya denunciado esos incumplimientos pero es verdad que a veces

sí sucedió así por parte de algunos comparecientes en dar una especie de escenario catastrófico de que no se ha hecho nada y se ha dicho aquí en los datos se ha reducido la siniestralidad laboral y claro que un solo accidente un solo accidente ya es grabe

para la familia de esa persona es el único lo único que le importa que solamente exista ese accidente para él ese es el único y yo con relación a la iniciativa original y aquí también

del marco propio de relaciones laborales porque es verdad que en este caso el partido nacionalista vasco no tanto pero bildu siempre aprovecha

para reclamar el marco propio de relaciones labores cuando hemos hablado también de negociación colectiva

yo me temía que a pesar de que había presentado esa enmienda usted conmigo no iba a hablar con este grupo por lo menos

que una de las condiciones que se iban a poner en la enmienda es esa reclamación del marco propio de relaciones laborales que se pide para todo

a una enmienda y sí lo hemos conseguido con el partido nacionalista vasco y con el partido socialista de euskadi que además creo que es una enmienda que se centra en el tema que hoy nos trae aquí que es poner medidas para intentar evitar los
accidentes laborales y la siniestralidad laboral nada más muchas gracias eskerrik asko llanos anderea euskal sozialistak sánchez anderea zurea

señor hernández evidentemente nosotros nos pusimos en contacto en primer lugar con

estaba mucho más centrada en la búsqueda de las soluciones en la línea que nosotros planteábamos y que creo que era la correcta evidentemente nosotros

un ámbito propio de relaciones laborales y que ese ámbito propio vaya a acabar con la siniestralidad laboral por el mero hecho de ser aprobado

a la hora de intentar acercar nuestras posturas como tampoco estábamos de acuerdo con el segundo punto que vinculaba cualquier tipo de ayuda económica que pudiera recibir una empresa por el mero hecho de que existe un incumplimiento dentro esa empresa en materia de prevención de riesgos laborales porque en primer lugar ayudas específicas por cumplir no existen no se dan no tenía lógica pero tampoco entendemos que cualquier tipo de ayuda de cualquier otro departamento se tenga que vincular a ese cumplimiento o no cumplimiento

injustas incluso poner en dificultad la viabilidad de alguna empresa

con lo cual no estamos de acuerdo y puestos de trabajo de trabajadores que no tiene por qué vincularse si aquí hay un incumpliendo para eso está un procedimiento sancionador

para poner la sanción que consideren pertinente luego dependerá también de la gravedad de la sanción porque existen

de tener que valorar la cuantía de esa sanción

ya lo valorará teniendo en cuenta los distintos factores y las distintas comprobaciones que haya efectuado

la señora otamendi ha señalado que no es cierto lo que se planteaba en nuestra enmienda transaccional de que los accidentes son evitables cómo que no

por supuesto que pueden ser evitables se pueden evitar poniendo las medidas adecuadas en muchísimas ocasiones que al cien por ciento a lo mejor no puedes evitar todos

la afirmación es perfectamente correcta porque sí pueden ser evitables y se evitan muchos no se puede definir estadísticamente cuantos accidentes

de valorar estadísticamente nunca se sabe todo lo que se ha podido evitar pero se evitan y están ahí y eso se hace a través de los requerimientos los asesoramientos y las actuaciones que realiza osalan

periódicamente por otro lado la señora otamendi ha indicado que no entendían por qué estaban metidas en un procedimiento en un concurso a nivel nacional las plazas

de inspectores de trabajo de aquí porque la inspección de trabajo sigue siendo un cuerpo nacional y los subinspectores de empleo y seguridad social y los inspectores que se crean ahora de seguridad y salud laboral son

y están metidos en concursos de ámbito nacional y se coordinan entre el gobierno vasco con el ministerio en madrid el ministerio estatal

las plazas vacantes que están aquí que quieren ser cubiertas se meten en esos concursos nacionales y cualquier inspector de ámbito nacional puede venir aquí como cualquier inspector que está

estando así y no se plantea ningún problema porque es un cuerpo nacional y tienen derecho también los inspectores de trabajo a poderse mover

o no transferidas pertenecientes al estado y por otro lado se habla siempre solo del número de inspectores existentes

evidentemente nosotros aquí siempre nos centramos en los inspectores

pero existen también inspectores no transferidos y están destinados también en esta comunidad autónoma vasca y son

trabajando no solo con treinta y ocho evidentemente aquí siempre hablamos solo de los inspectores transferidos

no solamente existen treinta y ocho y eso es bueno porque siempre

en el año dos mil dieciocho no se ha producido aquí nunca en la vida

por ello porque eso es un logro muy importante diecisiete plazas más

cuatro cuestiones muy rápidas primero nos hacía una pregunta sobre el marco propio de relaciones laborales

respecto a un marco propio de relaciones laborales no es ningún secreto

a la extensión del acuerdo del debate más a la extensión y lo veíamos en el debate anterior que incluso nos asustábamos el señor becerra y yo de los puntos que se acordaban en materia laboral se me ocurren cien mil historias sobre las que podemos acordar y ahora mismo

que estoy confeccionando en relación con esas comparecencias no solo relaciones laborales precariedad empleo estable riesgos psicosociales necesidad de sanciones coordinación importantísimas todas

fijan un poco el debate y realmente el debate el día de la interpelación quedó fijado en el ámbito de las estadísticas fundamentalmente de esas bases estadísticas yo así lo entendí y he leído

y ahora usted me dice que las estadísticas a usted que me ha asustado un poco no le sirven para nada

son la base las estadísticas son la base para determinar y en relación a lo que dice el señor hernández para determinar son la forma de medir y determinar en qué vamos bien y en qué no vamos tan bien esa es la esencia de esa herramienta conseguir ese objetivo en este sentido usted decía que veía el debate lamentable

lamentablemente y le he visto como un poco ahí alicaído

un debate que quizás ha pecado de eso de no haberlo concretado en algunos ámbitos y es una cuestión que podemos hacer debatir sobre ámbitos y que seguramente haremos no y decía usted señor hernández que se siga haciendo

no es bueno bueno que se siga haciendo en los ámbitos donde se está haciendo bien tampoco es malo incluso yo diría que es bueno hombre hemos conseguido o hemos encontrado la veta iremos por ahí no tiremos por la veta

y esas estadísticas nos dicen ámbitos en los que se están haciendo o nos dan pautas nos marcan entornos en los que

y para nosotros la clave y lo vuelvo a traer la clave sería dos la primera y he hecho referencia en mi primera intervención a ella

esa cultura preventiva que lo hemos visto en otros ámbitos

he hablado de la seguridad vial pero podemos hablar del ámbito del tabaco por ejemplo

normales hoy no nos parecen nada normales hemos cambiado hemos conseguido cambiar la cultura esta sociedad ha conseguido cambiar la cultura eso se puede hacer mucho en el ámbito de las relaciones laborales

y el gobierno está en ello y luego la segunda clave la participación de todos y de todas y

esta participación lo que estamos viendo es que en algún momento hay algunos agentes muy cualificados

a mi juicio que participar quizás porque yo he tenido una cultura de participar allí donde he podido participar he participado y si encima he tenido la consideración de ser un digamos

singular o con mucho que decir es cuando efectivamente he ido con muchísimas ganas de participar y ese es un